aldaketa aldaketa sakona eta beharrezkoa en el proceso de transición hacia este modelo de seguridad integral en el cual la seguridad sea un concepto

que ha apostado de manera decidida por incorporar nuevas capacidades tecnológicas para agilizar la respuesta a la ciudadanía

un canal adicional para que la ciudadanía pueda comunicar

partiendo del balance que hace del uso de esta herramienta por parte de la ciudadanía cuál es la previsión para incrementar sus capacidades eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna

la posibilidad de personalizar a la que antes he hecho referencia por ejemplo las categorías como violencia de género o agresión sexual

cuatro veces más incidentes que en el año dos mil veinte particularmente los calificados como violencia de género y agresión sexual sin embargo nos preocupa el hecho de que los avisos de emergencia

y eso pese a las campañas desarrolladas desde la administración pública conjuntamente con otras instituciones en puridad no llegan al uno por ciento ni del total de las llamadas atendidas por sos deiak ni del total

por ello seguimos mejorando el instrumento de manera que el año dos mil veinte usted ha hecho referencia a ello se implantaron en la app dos nuevas funcionalidades una muy interesante

que permite reducir drásticamente los tiempos invertidos en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas mayores senderistas y ciclistas solitarios etcétera lo cual mediante el acceso voluntario al track de los últimos minutos del trayecto permite identificarles con una rapidez que es fundamental

una segunda funcionalidad es el ciento doce inverso en el que ya no son las y los ciudadanos los que llaman al ciento doce sino que es la propia sos deiak

para enviar alertas tempranas geolocalizadas con el fin de prevenir situaciones de riesgo

relacionados con riesgos de emergencia química de cara al futuro

un estándar que permite a las aplicaciones de emergencia enviar información crítica al organismo que atienda

con independencia del lugar en el que se encuentre con lo que tenemos comunicación app con toda europa

y finalmente estamos adaptando funcionalidades para colectivos críticos y especialmente vulnerable

intentamos que distinga nuestra actuación contando incluso con mayoría absoluta

el acuerdo y la colaboración con los grupos de la oposición en este parlamento la deliberación y la aprobación de leyes permite contrastar la voluntad real de acuerdo entre los grupos parlamentarios y el gobierno muy especialmente cuando hablamos de los grupos que no sustentan al gobierno la reorientación del presupuesto de dos mil veinte o la ley de presupuestos dos mil veintiuno aprobadas en plena pandemia

el proyecto de presupuestos dos mil veintidós ofrece una nueva oportunidad y le invito a participar la puerta está abierta contamos con mayoría absoluta pero somos conscientes de la oportunidad de dialogar y voluntad de acordar eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gorrotxategi para justificar la pregunta

tiene el gobierno vasco para euskadi hace usted referencia al informe del banco de españa sobre el mercado de la vivienda y al elevado precio del alquiler en bilbao en donostia

que las medidas que se centra en incrementar de manera estable la oferta de vivienda en alquiler para su puesta a disposición de los colectivos más vulnerables son las más efectivas

el precio medio del alquiler en gasteiz mil ciento cuarenta y ocho euros en bilbao mil noventa y siete

a todo esto a la vez acompañado con unos índices de desahucios también escandalosos

en dos mil dieciocho mil ciento noventa y uno en dos mil diecinueve

etcétera es decir es verdad que se están haciendo cosas pero todavía hay muchas cosas que hacer y

con la ley de vivienda que se aprobará si tenemos en cuenta esta ley que se va a aprobar según datos del gobierno vasco de facto podría esta ley permitiría que se baje el precio del alquiler de al menos mil doscientos viviendas en euskadi

la cuestión es está dispuesto el gobierno vasco a llevar a cabo a utilizar este instrumento y declarar

los principales municipios turísticos para poder hacer efectiva esta ley

de los pequeños propietarios de viviendas alquiladas con incentivos fiscales la cuestión es está también el gobierno vasco dispuesto a coordinar el trabajo con las diputaciones forales para que esto puede llegar a ser efectivo es decir es verdad

incidir más en el precio de la vivienda que en euskadi es un gran problema y me gustaría saber si el gobierno vasco está dispuesto a aprovechar todos
los instrumentos que tiene en este momento para eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

y creo que es importante seguir constatando lo que se está haciendo aquí en euskadi en euskadi contamos con una política social de vivienda toda la vivienda pública se dedica al alquiler casi una de cada tres viviendas públicas que se han construido en dos mil veinte en el estado español se han construido en euskadi disponemos de un parque de alquiler social de veintiséis mil viviendas

el pago del alquiler el programa bizigune de alquiler social ha sido premiado como una de las iniciativas europeas más innovadoras más de dos mil doscientos jóvenes se han beneficiado de una subvención

cita usted también de alguna manera los desahucios que pudieran ser o en todo caso en españa han crecido un trece por ciento en el primer trimestre de este año

las viviendas vacías en euskadi representan un dos por ciento del parque total en españa el trece por ciento

y no menciono las exenciones fiscales que se hayan podido aplicar por parte de las diputaciones

en septiembre hemos aprobado una nueva orden de ayudas a la rehabilitación destinando treinta y tres millónes de euros anuales adicionales durante los próximos tres años y en definitiva euskadi dedica setenta y cuatro euros por habitante a la política de vivienda cuando la media en el estado es de cuarenta y uno

y acabamos de elaborar además el plan director de vivienda dos mil veintiuno dos mil veintitrés reforzando

le reconozco que existe un margen de mejora y estamos dispuestos a explorar con ustedes la oportunidad concreta que nos ofrece el proyecto de presupuestos del próximo año

lehendakari jauna egun on el culebrón de la llegada de la alta velocidad a euskadi es ya la historia interminable

y que progresa muy lentamente sobre el terreno en el año dos mil dieciséis con el gobierno de rajoy todo estaba claro

así seguía siendo cuando se aprobaron los presupuestos del año dos mil dieciocho y así dejó de ser

dejó de ser porque cada año de gobierno del señor sánchez ha supuesto un año de retraso

está claro en boca de los delegados del gobierno el señor loza a la sazón delegado del gobierno en aquel momento insostenible el esfuerzo inversor de mariano rajoy y el señor itxaso dice que son imposibles los soterramientos y lo más sorprendente certifican ustedes con su apoyo y con su voto cada retraso cada aplazamiento y cada incumplimiento ahora se habla

sin calendarios ni plazos para aquello que tan claro estaba hace tres años exige usted que sánchez cumpla con el tav pero todos sabemos que tener el ave en servicio en el dos mil veintitrés es ya imposible y de qué hablan entonces sus pactos con sánchez son mal negocio para los vascos

a todos los demás quieren aparentar que es el gobierno vasco quien trae el tav a euskadi pagado por supuesto por todos los españoles en realidad acabar el tav siempre les ha dado igual ahí están los retrasos tras pactar en su día

lo que importa es construir el relato de pnv y de un gobierno vasco que acabe la interminable obra y que se olvide

nos hablan hoy de cumplir lo presupuestado en el dos mil dieciocho tres gobiernos con idénticos socios y respaldos

rubor al interés de los vascos por eso le pregunto lehendakari

completamente de acuerdo pero claro para ser tan negativo algo más podría hacer porque mire lehendakari el tav estaba encarrilado como le he dicho en el dos mil dieciocho con el gobierno del pp y ustedes

lo han llevado a vía muerta durante todo este tiempo y esa es la realidad lehendakari cuando yo le pregunto por el nuevo retraso es porque hay un nuevo retraso

es decir la indefinición más absoluta y ustedes protestando en medios pero aceptando todo en despacho los ciudadanos son escépticos

en los pactos de gobierno de cada legislatura y algunos se jubilarán sin verlo en servicio

le van a seguir apoyando a ustedes les vemos aceptando provisionalidades indefinidas sobre las estaciones en las capitales y el todavía más indefinido soterramiento nosotros

que en euskadi en españa y en europa nuestro compromiso con la y vasca

y por lo tanto yo creo que debe asegurarse de que sus pactos y alianzas dejen de ser tan mal negocio para los vascos

que es completamente negativo todo lo que se está haciendo sobre esta cuestión

iturgaiz no valoro negativamente todo valoro negativamente el retraso en las previsiones de ejecución del tren de alta velocidad y la llegada del ave a las capitales vascas

lehenbailehen bukatzeko helburuarekin señor iturgaiz contamos con una experiencia eficaz en lo que al gobierno vasco se refiere así el gobierno vasco ejecutó

del gobierno vasco es absoluto y además eficaz en su ejecución

y su ejecución presupuestaria completa en todo caso el gobierno español es responsable de culminar una infraestructura de comunicación básica para la conexión con europa desde la puesta en marcha del tren de alta velocidad en mil novecientos noventa y dos en el estado español han cambiado muchas cosas y ha habido muchos gobiernos

como espacio de inversión y de apoyo por parte de las instituciones comunitarias el corredor atlántico es una oportunidad en este sentido en mil novecientos noventa y cuatro

la unión europea estableció el primer mapa de corredores ferroviarios transeuropeos de carácter prioritario

y en esa cumbre de essen en mil novecientos noventa y cuatro se estableció

la red debía estar operativa le puedo hablar también de las experiencias con el gobierno español presidido por el partido popular en todo caso el compromiso también del señor rodríguez zapatero desde el año dos mil seis

no obstante la actitud del gobierno vasco va a seguir siendo exigente con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y a su vez

espero contar con la colaboración de su grupo pero le pido memoria y franqueza dice usted que pedro sánchez ha incumplido los plazos comprometidos por rajoy de acuerdo

desde que se empezó a gestar este proyecto hace tres décadas se han acumulado los retrasos en una obra que debería y debe conectarnos con europa

como digo espero contar también con la colaboración de su grupo así como de los agentes sociales económicos e institucionales en la defensa del corredor atlántico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

a quienes se saltaron el confinamiento domiciliario la reacción de su gobierno mejor dicho las reacciones fueron contradictorias el uno de septiembre

las que no se habían abonado sin embargo se mostró firme en no anular las multas ya pagadas ni las recurridas esa fue la primera reacción después el día dos de octubre cambiaron de idea y anunciaron que sí devolverían el importe de todas las multas pagadas segunda reacción segunda versión

los ciudadanos vemos que un mismo gobierno en base a una misma sentencia ofrece dos lecturas diferentes en un intervalo de un mes su consejero de seguridad el señor josu erkoreka ha justificado este cambio de criterio en un análisis jurídico contrastado esto qué quiere decir acaso no hubo una lectura rigurosa objetiva y contrastada

desde vox entendemos que una decisión que afecta a miles de ciudadanos que fueron multados injustamente por una medida anticonstitucional y totalitaria del gobierno social comunista

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez pues efectivamente el motivo ha sido que nuestras decisiones

a nadie sorprende ya la improvisación de su gobierno lamentablemente los vascos estamos acostumbrados a los bandazos de su gobierno

es más la imagen formada por un gobierno es un gobierno de compartimentos estancos y esa es la única explicación posible para este episodio que deja en entredicho la rigurosidad de su gobierno a la hora de acatar las decisiones judiciales

desde vox ya se lo dijimos le advertimos ya hace un año que su gobierno no podía afrontar la crisis sanitaria económica y social que sufría el país vasco

y no nos equivocamos cito textualmente el gobierno vasco

no lo digo yo no lo dice vox lo dicen todos los medios de comunicación que les son afines esos que a nosotros nos silencian pero que tantos días de gloria han dado y siguen dando a su ejecutivo hasta ahora la única respuesta de este gobierno ha sido cargar contra los jueces cada vez que le desautorizan o en palabras del señor erkoreka viene un tribunal que lo echa todo por tierra basta ya de escudarse

libremente la pandemia ha sido la excusa del gobierno de la nación y de su propio gobierno

los medios de comunicación han demonizado a vox por decir que estábamos ante un estado de excepción encubierto y por recurrirlo ante el tribunal constitucional pero ya ven teníamos razón

el pleno del tribunal constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad formulado por el grupo parlamentario vox en el congreso

señor urkullu espero que esta vez haya visto las orejas al lobo y cuando llegue el pronunciamiento del segundo estado de alarma sean capaces de realizar un análisis jurídico
a la primera lo ha previsto ya el gobierno vasco qué va a hacer con el segundo estado de alarma cuando se vea que es también inconstitucional muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez qué va a hacer el gobierno vasco es que acaso conoce usted lo que va a ser la sentencia

en relación al pago de las multas impuestas por vulnerar restricciones a la movilidad durante el primer estado de alarma el gobierno ha explicado con claridad las razones de esta decisión y cito

situaciones no consolidadas originaría un agravio comparativo entre quienes abonaron voluntariamente el importe de la multa

en el momento en que hemos contado con todas las garantías jurídicas y de viabilidad para adoptar esta decisión señora martínez le recomiendo que atienda a las declaraciones de iñaki subijana presidente del tribunal superior de justicia del país vasco

me parece una decisión justa creo que la explicación ha sido muy coherente no podemos hacer de peor condición a quien ha cumplido la sanción que se le impuso

esta decisión se mueve muy en la línea del artículo cuarenta de la ley orgánica del tribunal constitucional por lo tanto estamos hablando de una decisión justa y ajustada a derecho

pero sí le aclararé que el treinta y uno de julio se publicó en el boletín oficial del estado la sentencia dictada por el tribunal constitucional el catorce de julio que el gobierno vasco no ha sido parte en el procedimiento y por lo tanto

y desde ese momento los servicios jurídicos del departamento de seguridad convinieron en la necesidad de que cualquier medida que se adoptase debía hacerse con la mayor seguridad jurídica posible partiendo de esta premisa se han adoptado tres decisiones consecutivas

decisión del consejo de gobierno de poner fin a las actuaciones pendientes en vía judicial y posteriormente y como consecuencia del debido contraste jurídico

esta decisión se ha adoptado en el momento en que hemos contado con la seguridad jurídica suficiente señora martínez el reintegro por otra parte va a generar

al igual que sucedió en el momento del cobro en todo caso el propósito de este gobierno en lo que a la imposición de multas durante la pandemia se refiere nunca ha sido recaudatorio el objetivo de este gobierno siempre ha sido preservar la salud de la ciudadanía vasca y para ello

muchas gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días a todos

interpelación porque yo creo que es una cuestión concreta y está claro que cuando aparecen en los medios de comunicación

en el gasto corriente de la administración no suelen sentar bien a la sociedad

cuando ese gasto además se concreta en altos cargos personal de confianza o cualquier tipo de personal

dependiendo además de los momentos y de las circunstancias sociales de crisis o de situaciones complicadas que se viven pues gustan muy poco también no por supuesto que en lo que se refiere a los altos cargos

todo eso lo decide el lehendakari lo decide

y por supuesto que también entendemos que debe de haber altos cargos

también vemos que esa nómina se ha incrementado mucho con este gobierno y se ha incrementado mucho en lo referido a altos cargos de la administración general los consejeros viceconsejeros directores personal con rango

ha llevado a lakua a alcanzar un record de altos cargos y eso es una cuestión que está ahí por lo que sí que nosotros pedimos explicaciones el incremento del gasto en altos cargos de la administración general de euskadi respecto a dos mil trece que fue el primer gobierno los primeros presupuestos

ha sido del veinticinco coma cuarenta y siete por ciento es decir de los

euros o sea que casi tres millónes más a los trece millónes setecientos

de altos cargos de la administración general de euskadi lo cual eso sí verdaderamente importante pero nosotros también

y el gasto del gobierno vasco en altos cargos en dos mil veintiuno y va a ser como mínimo de veinticuatro millónes ochocientos cincuenta y seis mil euros o sea es una cantidad muy importante altos cargos de la administración

y un montón de empresas entes sociedades públicas con altos cargos o sea nos da como mínimo veinticuatro

y no hemos podido computar además en esa cantidad que será mayor

al no disponer de esos datos concretamente no los hemos podido disponer no están publicados es decir bueno pues trece millónes setecientos mil de la administración más

más un montón de entes hasta cuarenta y dos de empresas y de sociedades hacen esos

está claro que es una cifra muy grande muy importante en relación con lo que son altos cargos

tenemos que interesarnos por esa cuestión está claro que estamos en la antesala de la presentación de los presupuestos generales para dos mil veintidós y es posible que esa partida de altos cargos siga in crescendo

del gobierno está en las manos del lehendakari está en las manos del consejero de hacienda está en las manos

si se va a seguir incrementando ese récord no vamos a seguir batiendo récords en la nómina de altos cargos no y ese récord de

en la estructura del gobierno se está produciendo además en plena que es lo importante cualitativamente

es decir después de las elecciones de dos mil veinte y con la conformación del

entendemos a otros ámbitos de actuación más ligados a actividades de recuperación que a incrementar personal directivo

está ahí y por eso como decía y se lo oímos

del desproporcionado aumento del gasto en

injustificado incremento de los mismos después de las elecciones del dos mil veinte yo utilicé la palabra desproporcionado o injustificado efectivamente no lo decían las noticias pero

en plena crisis social y económica en la que es necesario destinar más recursos económicos

y menos a gasto corriente en este tipo de gasto corriente al que me refería esas son las cuestiones esa es la situación y por eso mismo yo le planteo la interpelación no les planteo la interpelación

el gobierno vasco ha incrementado en este momento de tal manera la nómina de altos cargos del gobierno vasco por qué

que nunca en el gobierno vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

gauzak ondo azaltzen saiatuko naiz decía que de entrada querría poner de manifiesto que todos los datos de los que le hablo están publicados en nuestro portal de transparencia y son de uso público este gobierno está comprometido con la transparencia no tienen nada que esconder

alineado con los altos estándares de calidad que marca la buena gobernanza como decía la información del número de puestos de personal que de conformidad con el artículo dos punto uno de la ley uno barra dos mil catorce reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos tiene tal condición es pública y está publicada como consecuencia de nuestro compromiso con la transferencia anualmente desde el año dos mil quince se da publicidad a dicha información

de la comunidad autónoma de euskadi concretamente en la última actualización de dicho documento se realizó en junio de dos mil veintiuno

señor barrio ya que la desproporción que usted plantea en el tenor literal de su interpelación se identifica expresamente con el número de altos cargos y su evolución conviene aclarar de partida que alto cargo es aquel que define la ley siete barra ochenta y uno de treinta de junio sobre la ley de gobierno

viceconsejeros viceconsejeras y las y los directores que se designarán por decreto y están vinculados a la comunidad autónoma por una relación de servicio no obstante tal y como se le ha informado por escrito los datos publicados por el gobierno coinciden con los de las plantillas presupuestarias según las cuales

existen ciento noventa y cuatro puestos de altos cargos entre estos se incluyen además de los miembros del gobierno y demás altos cargos conforme a la ley siete barra ochenta y uno

y la delegada de protección de datos que son categorías asimiladas a altos cargos a efectos presupuestarios estamos hablando de un incremento de doce altos cargos un seis coma seis por ciento de aumento

muy lejos de los números que usted sostiene por otro lado usted alude en su interpelación al elevado gasto presupuestario en altos cargos y exaltos cargos

primera no ha habido incrementos retributivos más allá de los aprobados en la propia ley de presupuestos que como conocen y con carácter general es del cero coma nueve por ciento la diferencia retributiva de altos cargos con el mismo rango corresponde a la antigüedad a la que tienen derecho algunos de ellos por su condición de personal funcionario o laboral

las pensiones vitalicias de los miembros del gobierno vasco están reguladas en la ley siete barra ochenta y uno

que limitó los supuestos que dan derecho a recibirlas y las cuantías de estas pensiones se establecen el artículo treinta y ocho de dicha ley siete barra ochenta y uno insisto que son datos que usted ya conoce no solo por ser públicos sino porque se le ha dado cumplida respuesta por escrito a sus diferentes solicitudes de información

y que en ningún caso arrojan resultados desproporcionados las funciones de todos y cada uno de los puestos reservados a los altos cargos de este gobierno están publicadas con detalle en cada uno de los decretos de estructura orgánica aprobados por el gobierno pero además de esta justificación de índole más funcional

subrayables que justifican amparan y aconsejan este proporcionado incremento primera dar respuesta a una crisis sanitaria económica y social sin precedentes

como usted bien sabe las administraciones públicas están jugando un papel fundamental en este momento la ciudadanía demanda de los gobiernos soluciones a los problemas soluciones situadas dentro de un marco de responsabilidad presupuestaria que exige

esto es necesario para poder afrontar retos de cada vez mayor complejidad

que acabaría azotándonos una crisis de salud a escala global una crisis sanitaria que ha acabado afectando a todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida ya sea de manera directa o indirecta por lo tanto

ha sido preciso reforzar los puestos de responsabilidad directiva para dar respuesta a los efectos de la pandemia en todos los órdenes de gestión del gobierno segunda razón la gestión de nuevas competencias usted es consciente de la asunción por parte de euskadi de competencias contempladas

algunas de ellas de gran calado como la transferencia de gestión de centros penitenciarios que va a requerir de recursos humanos adicionales esperamos además que por fin tras más de cuarenta años acabe culminándose el proceso transferencial

sobre las que asumir la gestión desde el gobierno vasco y tercera y última razón la gestión de los mayores presupuestos públicos de la historia este próximo año según he adelantado los presupuestos del gobierno vasco se prevé que superarán la cifra

y además será preciso canalizar y ejecutar

que requerirán de una capacidad de impulso y ejecución presupuestaria adicional a los recursos humanos actualmente existentes

que asuman la responsabilidad pública que dicho compromiso supone a todos los niveles

al escrutinio de la ciudadanía y al juicio y valoración de la oposición representada en esta cámara esto da lugar a hablar de un incremento desproporcionado e injustificado de altos cargos sinceramente

es más creo que es necesario poner en valor y dignificar el compromiso que hoy en día y en situaciones excepcionales como las que nos ha tocado vivir están dispuestas a asumir estas mujeres y hombres con profunda vocación de servicio público

más situación complicada más altos cargos pues no entendemos que eso deba de ser así

más altos cargos el que haya más crisis o situaciones complicadas ya hay altos cargos y ya hay personal funcionario con labores directivas perfectamente capacitado para ir gestionando y además usted no ha hablado de la sanidad usted ha hablado en todos los órdenes de gestión del gobierno no en todos los órdenes de gestión del gobierno no

el incremento de altos cargos unido a la crisis no puede ir en esa lógica que usted nos presenta nosotros señor lehendakari hacíamos

cuando es así nuestra labor de oposición tiene que ser controlar al gobierno en esa materia en entender que si se hincha la nómina de altos cargos cuando siempre hemos tenido un buen número muy importante de altos cargos

del pacto de gobierno o de lo que sea pero hemos visto eso no porque ustedes

el partido nacionalista vasco criticaron mucho a patxi lópez cuando hizo su gobierno en relación con los

se criticó mucho algunos parlamentarios compañeros compañeras de esta cámara se acordarán de esto y sin embargo

que se hicieron en su momento y yo lo cuento en este momento como una anécdota pero

como miembro de la oposición es analizar estas circunstancias de verdad nosotros hemos hecho un trabajo en relación con los cargos altos cargos y todo el personal

porque hacen funciones de altos cargos y está bien claro y hemos analizado

los seis millónes de osakidetza vuelvo a decir en relación con los altos cargos y después

estructuras hasta cuarenta y dos algunas vuelvo a decir no hemos podido obtener la información

por supuesto el ente público e i te be spri la academia emakunde sprilur ihobe hazi es decir dónde están

veinticinco millónes de euros lo que hemos computado y vuelvo a decir que algunas no están en esta relación yo cuando quiera le dejo la relación porque lo conocerán toda ustedes

del análisis que hemos hecho de los presupuestos y desde luego

hay más tiene más altos cargos ahora que cuando usted

inició en dos mil trece la andadura como lehendakari con los presupuestos y hay más o sea se ha incrementado esa nómina

y eso está ahí y entendemos que en un momento de crisis lo que hay que contener es eso para otro tipo de recuperación es una labor de oposición usted ha hablado de ha mencionado algunas cuestiones también que en

demagogia usted ha hablado incluso de intenciones ocultas con la

cómo trabaja el gobierno saber qué cuenta da a este parlamento de las decisiones que da de incremento de altos cargos

es mi obligación interpelar al gobierno en relación con este tema y tampoco es una cuestión de transparencia

ya está eso está asumido tiene tenemos que saber todos

todos nosotros y toda la sociedad es una cuestión desde nuestro punto de vista de prioridades del dinero público y de entender en este momento que hay un sobreincremento de gasto en altos cargos y todo ese personal

que funciona en clave de alto cargo en la administración y eso desde luego

entendemos que presentaremos una moción para pedir primero una claridad una mayor claridad no le digo

claridad presupuestaria en relación con este tipo de altos cargos y personal designado por

en todas las empresas públicas o participadas y entendemos que nuestra

es pedir que haya más contención en momentos de crisis es decir una lectura contraria a la que usted ha hecho muchas gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

o en respuesta a lo que es la legislación a la que nos atenemos en todo caso se le responde a usted a las preguntas sí o no se le dan las explicaciones que formula sí o no yo creo que se les responde a todo

todavía aclararle más algunas de las cuestiones que usted ha recibido ya como respuestas

del año dos mil ocho con el gobierno del partido socialista de euskadi monocolor apoyando al gobierno y que supuso que en el año dos mil doce

en un veinte por ciento la nómina de altos cargos del gobierno vasco en un veinte por ciento también

con respecto al año dos mil doce y creo que no tiene nada que ver con la crisis sanitaria y crisis económica que ahora estamos padeciendo

como ya le he señalado señor barrio estamos a las puertas de presentar los presupuestos más expansivos de nuestra historia unas cuentas que en su gran mayoría

también destinadas a incrementar el esfuerzo en el ámbito de lo social esfuerzo en políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía políticas públicas

en un número proporcional a la exigencia a la que nos enfrentamos con el objetivo de dar respuesta a los nuevos tiempos que nos interpelan con nuevas preguntas aún sin respuesta cada momento y cada situación requieren de respuestas y soluciones diferentes y si es necesario adecuar nuestro modelo de gobernanza y de gestión

inversión en políticas públicas que a buen seguro revertirá en beneficio de toda la sociedad vasca este gobierno con su lehendakari y consejeras y consejeros a la cabeza

ejecutivo comenzó su andadura hace poco más de un año entonces ya éramos plenamente conscientes de la crisis

en los cuatro años que se iniciaban como creo que lo tuvo que ser el gobierno del año dos mil ocho dos mil nueve perdón apoyado por ustedes el gobierno

invariable el número de departamentos respecto de la anterior legislatura once

se ha visto incrementado en un total de doce en términos relativos estaríamos hablando de un alto cargo más respecto a la anterior legislatura por cada departamento este sería el incremento desproporcionado e injustificado al que usted alude y le diré aún más en el conjunto de los cargos públicos de la administración que incorpora a personal directivo

además de personal eventual con consideración de cargo público este incremento entre la anterior y la actual legislatura está en torno al tres por ciento usted considera injustificado y desproporcionado el actual gasto en altos cargos y yo afirmo que estamos ante una cantidad ponderada

que la gestión exige más aún en una situación de crisis económica y sanitaria cada una de las mujeres

respondemos ante toda la sociedad de la buena gestión de los servicios y áreas de actuación que los decretos de estructura

cada alto cargo de este gobierno por tanto está justificado por las funciones y responsabilidades de las que debe responder

a casos como el de josé luis bilbao o sin echar demasiado la vista atrás hay que recordar el salto de la señora bengoetxea a e i te be en cuarenta y ocho horas de la diputación a e i te be

de la noche a la mañana que pasan de gestionar la sanidad pública a defender los intereses de la sanidad privada pero centrándonos en el lobby del ámbito del lobby energético que nos ocupa este mismo año quien fuera asesor suyo de confianza señor lehendakari el señor juan diego ha pasado en apenas tres meses

repsoleko kontseilaria y a estos ex cargos públicos del pnv hay que sumar toda esa gente destacada del partido los arrieta san pedro berroeta que copan los consejos de administración de

que quede claro que nosotros y nosotras no estamos en contra no estamos en contra del legítimo salto profesional a la empresa privada

y viceversa que quede claro eso sí con regulación

lo que estamos en contra es de estas puertas giratorias que se dan en este país sobre las que

toca alzar la voz para que cambien las cosas por higiene democrática y para que entre otras cosas como estamos viviendo esta semana algunos dejen de defender

oligopolio de las eléctricas a costa de las clases populares

izquierda unida las posiciones que su gobierno así como su partido han ido manteniendo a lo largo del tiempo en relación con el oligopolio energético

grupo parlamentario en el congreso de los diputados en la tramitación de la ley de cambio climático y las enmiendas que presentaron entre ellas el mantenimiento de la exploración de gas

del diesel así como sus posiciones recientes en relación con el real decreto que ayer se tramitó en el congreso de los diputados y que su posicionamiento finalmente fue la abstención incluso anunciando que cuando vaya como ley al congreso votarán en contra y la razón fundamental

últimos días en relación con su posición ha tenido que ver con el impacto y la repercusión que iba a tener este real decreto en la en las empresas a razón del tope o del límite de los beneficios ilegítimos que el oligopolio energético ha venido disfrutando

del tiempo a nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos ezker anitza lo que nos preocupa es que

la razón por la cual el posicionamiento de su grupo parlamentario y de su gobierno es

tenga a razón de ser las relaciones estrechas que mantienen exmiembros de la administración pública vasca o de su partido con el propio oligopolio energético y a razón de esta cuestión es por la que le hemos formulado

las personas que hayan ocupado cargos de alta responsabilidad en las administraciones públicas vascas que después ingresen en los consejos de administración de grandes empresas energéticas eskerrik asko

en lo que es la mención a nombres apellidos de determinadas personas que puedan participar en consejos de administración de empresas energéticas que se mire también a su propia casa señor soto

habla de un posible conflicto de intereses cuando no tiene certeza de que exista usted cita nombres de personas concretas tratando de vincularlos con una irregularidad de la que usted mismo duda y esta estrategia para mí se asemeja

de la administración pública vasca o de su partido que ahora forman parte de consejos de administración le invitaría a que en cualquier caso ya que ha mencionado que nuestro partido o vinculados a nuestro espacio político forman parte de esos espacios lo dijese porque

estaría bien pero en cualquier caso sí que nos parece que

y la connivencia que pueda haber entre ex altos miembros de la administración pública vasca con

energéticas o de gasísticas de este país puede conllevar a que las posiciones de su partido y en su caso de su gobierno

meses y años han sido y prueba de ello también es la posición que mantiene su gobierno en relación con las colaboraciones con determinadas

solares en determinadas zonas protegidas de álava o proyectos de inversión muy concretos

y energéticas de este país pero también caso ejemplificante de lo que menciono respecto a posibles conflictos de interés

recientemente presentado y puesto encima de la mesa que no se hubiese dado en ningún caso

informaciones privilegiadas por miembros que a día de hoy ocupan responsabilidades en determinados cargos de la administración a determinadas consultoras en concreto y por tanto

de la administración y de la política y a razón de ello a su vez y se ha puesto el ejemplo antes de la falta de carencia en elección del próximo o próxima presidente o presidenta del tribunal vasco de cuentas públicas conlleva

un descrédito en relación con la posible práctica de determinadas

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor soto es usted quien ha mencionado a personas y le pido por lo tanto que sea usted quien haga memoria

en todo caso sobre las empresas consultoras también yo creo que ya hemos dado respuesta en este mismo pleno

el gobierno y esta cámara señor soto han regulado desde dos mil catorce el conflicto de intereses e incompatibilidades la ley regula

además el consejo de gobierno aprobó en dos mil dieciséis el decreto que desarrolla reglamentariamente esta ley incluyendo las obligaciones y los derechos

los sujetos obligados por la ley que intervengan en la adopción de decisiones relacionadas con asuntos en los que

e intereses privados propios o compartidos con terceras personas

y establece también que el personal cargo público durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrá iniciar relación laboral o mercantil con empresas sociedades o cualquier entidad de naturaleza privada con los que hubiera tenido relación directa no entiendo que pregunte por una valoración de un posible conflicto de intereses

si no existe es exigible un mínimo de prudencia y respeto si usted tiene de cualquier duda puede formular consultas y plantear quejas

ante la comisión del código ético se puede hacer desde cualquier instancia tenemos un marco normativo y un procedimiento de seguimiento y control para su verificación también tiene usted la opción del recurso a los tribunales cuando sin disponer de certezas se pone el foco de la acusación en personas concretas

en nuestra labor señor soto es más en la práctica se está dificultando el acceso a la responsabilidad pública de personas

su labor en la universidad en la empresa en los medios de comunicación en entidades en asociaciones o el tercer sector social

en lo contrario creo en la cercanía y en la relación entre las instituciones y la sociedad civil

no puede ser causa de sospecha o inhabilitación para otra responsabilidad pública o privada siempre que se cumpla la legalidad y le puedo asegurar que el gobierno es el primer interesado en que se cumplan los principios éticos establecidos no solo a conflictos de intereses e incompatibilidades también los referidos al respeto institucional a la transparencia a la responsabilidad y a la ejemplaridad eskerrik asko

señor azpiazu en primer lugar permítame que le agradezca aquí públicamente que comparezca ante este parlamento

en junio señor azpiazu nos envió un documento a los portavoces de economía sobre las directrices económicas para la elaboración de los presupuestos con un cuadro macroeconómico es decir de las grandes cifras que ha quedado más que desfasado como entiendo que ya

cuáles son las directrices económicas reales que está empleando su departamento para la elaboración del presupuesto muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari sailburuok muchas gracias señor gordillo reconozco siempre es interesante debatir con usted sobre cuestiones económicas

entre el cuadro macroeconómico de las directrices presupuestarias aprobado por el gobierno

el informe definitivo del segundo trimestre de la economía vasca ambos reflejan la situación de la economía y las previsiones

el que se utilizará para la elaboración del presupuesto del gobierno vasco para el año veintidós será el del segundo trimestre que es el último disponible

la mejor información y la más actualizada con la que se puede contar es más

le diré que el cuadro macroeconómico del segundo trimestre le refleja la mejora experimentada por la economía vasca en los últimos meses

interanual del dieciocho coma seis por ciento con todos los sectores principales de la economía vasca creciendo intensamente en sus cifras de valor añadido

el crecimiento esperado para el presente año se mantiene en la misma cifra que se dio con los datos del primer trimestre un crecimiento en términos reales del seis coma siete por ciento del pib y se incrementa siete décimas la tasa de crecimiento

para el año dos mil veintidós hasta el seis coma cuatro es cierto también que como siempre y más en estos momentos de especial zozobra económica las previsiones están sujetas a contingencias que son a todas luces difícilmente predecibles evolución de la pandemia tensiones inflacionistas suministro de materias primas

se utilizará como referencia para el presupuesto del año veintidós ha sido avalado por la ciencia independiente de responsabilidad fiscal

poniendo de relieve la prudencia de las estimaciones realizadas y garantizando que se satisfacen los requisitos por la normativa europea y además quiero decirle que este consejero está

eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza muchas gracias señor consejero le voy a recordar lo que ha sido

le llevo haciendo preguntas a su departamento que por cierto también agradezco que

lo cierto es que están bastante elaboradas a diferencia de otros departamentos o por ejemplo presidencia del gobierno mire señor azpiazu usted elaboró los presupuestos con una previsión inicial

al seis coma siete por ciento prácticamente tres puntos desde lo que inicialmente se consideró sobre el barril el precio del barril brent ya le pregunté en una ocasión

y por tanto habrá una corrección mire usted hizo una previsión con el barril brent a sesenta y uno dólares y ya va por ochenta y cuatro

no se está recuperando al ritmo que se prevenía bueno

en cuanto a la revisión de las previsiones del veintiuno pues otra vez tuvo que ir haciendo cada vez que se publicaba un termómetro de la economía vasca tuvo que hacer una corrección a la baja en cuanto a los tipos de interés veo que es un tema que no le preocupa sobre todo porque claro hasta que no se

que tendrán que pagar las generaciones futuras en cuanto al incremento del precio de la electricidad también le pregunté y tampoco le dio demasiada importancia en su momento

decía usted ahí que esta es una cuestión

no tiene o no considera su departamento que esta cuestión vaya a afectar

sea importante y por tanto será relativamente pequeña pues hombre ya me dirá usted cómo está la situación porque lo cierto es que

reestructuraciones etcétera le pregunté también por el aumento de las materias primas

que era un tema capital y oiga hemos visto que hay empresas también que han visto interrumpida su producción están realizando ajustes importantes

porque ciertamente no son suficientes le pregunté también por el desabastecimiento

no era una cuestión que preocupara en ese momento y que poco a poco se irá corrigiendo la cosa hombre yo

para que estas cosas no ocurran porque nos acaban perjudicando a todos cómo arreglamos esto señor azpiazu al final es decir nosotros hacemos un presupuesto

de unos indicadores que son muy favorables pero claro luego se da cuenta

y luego dejando de ejecutar inversiones le pido señor azpiazu que nos traiga un presupuesto

y en definitiva un presupuesto que sea transparente en definitiva señor azpiazu

me temo que no será el único que pueda variar sus previsiones económicas pero yo en eso soy keynesiano

el cuadro macroeconómico que le voy a presentar es el mejor que puedo presentar no es importante para todos que marquemos las directrices además del presupuesto de un escenario

ponen el foco en aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que ofrece la llegada

aprobar un presupuesto expansivo que por un lado consolide la salida de la crisis y repare los impactos de la pandemia

lance un ambicioso plan de inversiones como el que va a contemplar

conseguir como usted dice su apoyo o al menos su acercamiento inicial priorizan el esfuerzo del sistema sanitario van a atender las necesidades de los hogares y colectivos más necesitados

el apoyo al tejido empresarial y particularmente a las pymes el fortalecimiento de las políticas activas de empleo y de formación y la apuesta por el empleo de calidad

sostenible un modelo que refuerce el potencial de creación de riqueza y de creación de empleo de calidad y una economía que avanza hacia la digitalización

y contribuyendo al reto del calentamiento global un modelo que en

establezca una apuesta cada vez más firme y decidida por las personas en eso estamos señor gordillo le esperamos en la tarea eskerrik asko

que ha estado muy presente en los últimos meses en los noticiarios vascos debido a varios conflictos laborales pero también debido a la incertidumbre que ha supuesto la operación de compraventa de la empresa por la que rolls royce accionista único desde hace unos años pretende desprenderse de este activo

se ha pronunciado al respecto anunciando su disponibilidad para invertir en la operación hasta doscientos millónes de euros siempre y cuando

en nuestro territorio y se mantengan los puestos de trabajo el empleo

el mantenimiento del arraigo de la empresa al territorio

que desde luego en opinión de nuestra coalición sería un error pero sí hay en estos momentos desde luego contrastada una importante amenaza sobre el mantenimiento del empleo puesto que la compañía está planteando importantes despidos colectivos en los últimos meses como usted conoce bien pcb la conoce usted también es una de las importantes patas de este grupo en euskadi

y trabajadores a través de un expediente de regulación en las plantas de barakaldo

único objetivo en opinión de los sindicatos opinión a la que desde luego nuestro grupo se suma parece ser hacer más atractiva la venta del conjunto

hay ya cuatro sentencias en los tribunales que lo declaran nulo dando la razón a la plantilla sin embargo parece que la empresa

incluso en contra de estas sentencias judiciales por eso mantiene un recurso contra las sentencias y también

trabajo a nosotros nos parece que esto es criticable desde un punto de vista político y pensamos que el gobierno vasco debería ser especialmente contundente respecto al tema en un momento donde se están planteando la entrada en la empresa

si la empresa logra su objetivo la operación de inversión del gobierno vasco no cumpliría con ese requisito que ustedes mismos han puesto como condición el mantenimiento del empleo se partiría por el contrario de una inaceptable situación de destrucción de empleo cualificado en este caso en la empresa pcb más de ochenta empleos

de los cuales no podemos olvidarnos hay más de ochenta personas y sus familias por eso creemos

la inversión pública anunciada con la ejecución de esos despidos tal y como pretende la empresa y por eso pensamos que es necesario saber qué opina y qué va a hacer el gobierno vasco ante los mismos y ante la acción y ante la actitud de la empresa teniendo en cuenta las sentencias judiciales que declaran nulos esos despidos

también para criticar la actitud de la dirección de la empresa y para decirle a los directivos de

que no es aceptable lo que están haciendo aprovechamos esta tribuna para decirle a la empresa públicamente que debe retirar el recurso y reingresar a las trabajadoras y trabajadores a sus legítimos puestos de trabajo

utilizándolos como moneda de cambio para hacer más rentable una operación de venta en estos momentos cuando los tribunales han sentenciado que los despidos no proceden que son contrarios a derechos que son despidos nulos y que los trabajadores deben recuperar sus empleos pero no es relevante lo que opine nuestra coalición

es el gobierno vasco quien debe decirles esto de manera clara y pública y junto a ello actuar en la operación de entrada en la empresa para que se retire el recurso y se readmitan a las trabajadoras y trabajadores en sus puestos de trabajo recientemente

estuvo en la comisión de trabajo y empleo de este parlamento para exponer su situación seguramente usted lo conocerá en su comparecencia criticaron que mientras usted planteaba la posibilidad de adquirir una participación mínima

condicionándola al mantenimiento del empleo no ha expresado en cambio en ningún momento su oposición a la actitud de la empresa que no tiene intención de acatar las sentencias y además de plantear un recurso en contra de las mismas tiene en casa en estos momentos a las trabajadoras y trabajadores sin reincorporarles a sus puestos de trabajo

sino en contra de las decisiones de la justicia se preguntaban las trabajadoras los trabajadores nosotros aprovechamos a preguntarnos y a preguntarle a usted

el derecho al trabajo tan esgrimido por esta consejera por usted misma en sus críticas en más de una ocasión a las acciones de los piquetes en diferentes huelgas que se han llevado a cabo en esta

en los últimos meses pensamos señora consejera que esta sería también una buena ocasión para que usted y el gobierno al que pertenece reclamen el derecho al trabajo

a las que mantiene en casa sin permitirles trabajar los representantes de los trabajadores lanzaron también la siguiente cuestión en este parlamento en el caso de que las sentencias hubieran sido favorables a la empresa qué habría dicho el gobierno vasco al respecto nosotros no tenemos la respuesta pero

lo mismo pensamos que se le debe exigir al gobierno vasco más si efectivamente

pedir respeto y cumplimiento de la sentencia pero pedir respeto y cumplimiento de las sentencias en este caso

y decirle que reincorpore a sus puestos de trabajo a las y los trabajadores de manera inmediata nos gustaría señora consejera que su departamento

porque hasta la fecha no parece que así sea desde luego esta es la impresión que tienen las y los trabajadores cuando han pasado por esta casa más bien parece que como de costumbre no van a enmendarle la plana a una actitud que en nuestra opinión no es aceptable no es aceptable no porque lo digan los representantes de los trabajadores sino porque viene pensamos con el aval de unas sentencias judiciales que dicen que ese despido colectivo es nulo y que por lo tanto las y los trabajadores deberían estar ya hoy en sus puestos

a participar en el accionariado de esta empresa siempre y cuando se mantenga el empleo si a su vez no es capaz de adquirir un compromiso con ese empleo

grupo empresarial en este caso además no se trata de una simple ayuda

costo económico para las arcas públicas y por eso pensamos que se tiene que hacer con planteamientos estratégicos que vayan más allá de ayudar a una empresa implantada en euskadi

y el empleo pensamos que se tiene que hacer con el objetivo de tener capacidad de decisión sobre la propia empresa en favor del interés general interés general que desde luego en nuestra opinión

el empleo pero también la defensa de las personas que en estos momentos ya son parte de las plantillas del grupo nosotros estamos de acuerdo con la inversión pública en empresas

en concreto en esta empresa pero siempre condicionándola no solo al arraigo social sino también al mantenimiento del empleo al respeto de los derechos de las y los trabajadores y a la capacidad de intervención en la toma de decisiones empresariales porque esto último es fundamental para todo lo anterior la preocupación de la plantilla de pcb es evidente tras el acuerdo de compraventa entre rolls royce y bain capital un fondo buitre

a qué viene a sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible caiga quien caiga

hechos pero dentro de estos hechos también espera algo tan sencillo como que el gobierno vasco exija públicamente a la empresa que retire la amenaza que supone ese recurso y que reincorpore inmediatamente a estas trabajadoras

la cuestión clave seguramente será saber cómo va a hacer efectivo el gobierno la participación en esta empresa y qué mecanismos

de trabajo pero hay una cuestión previa en estos momentos es cuál es el compromiso de este gobierno con quienes ya son parte de esta empresa y de este grupo

están en riesgo a pesar de sentencias judiciales que dicen que deberían estar en sus puestos de trabajo nos parece que esa es la prueba del algodón previa a saber cuál es el compromiso real de este gobierno con el mantenimiento del empleo cuando anuncia una inversión en una empresa

egun on guztioi abrimos el debate señor hernández en este caso

en el conflicto laboral sobre todo tras haberse judicializado y como usted bien dice el tribunal ha emitido sentencia en favor de las personas trabajadoras

algo que usted decía los trabajadores y trabajadoras comparecen en la comisión de trabajo y empleo porque es la que ostenta la competencia en las relaciones laborales sin embargo sí le diré que en todo caso como es habitual

ha mantenido no una ni dos sino numerosos encuentros con representantes de los trabajadores en el comité de empresa para escuchar para atender sus circunstancias y facilitar la coordinación con el departamento de trabajo y empleo

en ese caso buscando los cauces que hagan falta para entablar un proceso de acercamiento

que es de lo que se trata porque de verdad el diálogo sincero y el acercamiento entre las partes con voluntad de acuerdo es la única manera de resolver cualquier tipo de conflicto y lo hemos visto recientemente en un conflicto que ha durado muchos meses que también se ha judicializado y se ha encontrado el camino para buscar solución y le quiero recordar en este sentido un aspecto y es que desde el gobierno vasco no solo desde el departamento creemos en un modelo inclusivo y participativo de la empresa en un modelo que además se ha aprobado por unanimidad en esta cámara en septiembre de dos mil dieciocho un modelo de empresa

que esté abierto a cambios y a la implantación progresiva de acuerdo a la realidad concreta de cada empresa un modelo donde trabajadores equipo directivo y propiedad comparten proyecto de desarrollo tanto de la propia empresa como los proyectos de desarrollo personal de todos las trabajadoras de esa empresa donde la relación de confianza de transparencia de comunicación son parte intrínseca del modelo de gestión que se aplica de forma

es un modelo en definitiva que permite avanzar hacia esa economía moderna transformadora con empleos de calidad que usted citaba

y cuando hablamos de conflictividad laboral tenemos que hacer referencia a algo que compartimos los que estamos en esta cámara compartimos desde el gobierno y tenemos que ser también proactivos en el llevar este tipo de actuaciones para la solución de esos conflictos laborales

en el que se trabaja en el sector aeronáutico vasco en estos momentos lo hablábamos ya allá por febrero marzo creo recordar a una pregunta que también se hacía desde eh bildu

y señalar que el sector aeronáutico vasco es uno de los más relevantes en este momento en nuestra y que tiene un posicionamiento además notablemente bien ubicado en el ámbito internacional tenemos

aciturri sener alestis y además

no me quiero olvidar y usted tampoco seguro de una significativa y extensa red de pequeñas y medianas empresas centros tecnológicos de toda la cadena de valor que dependen

esas empresas las pequeñas y las tractoras tenemos que trabajarlo de forma conjunta para desde luego tener una cadena de valor de futuro donde además tenemos otros sectores y lo hablábamos en aquel momento como el de la máquina herramienta

que son imprescindibles para que el sector aeronáutico también florezca por tanto

todo el sector aeronáutico si además consideramos el contexto en el que nos encontramos además de esas particularidades societarias en las que se producen cambios como en el de itp en este momento donde

tenemos que tener en cuenta que el sector aeronáutico en su conjunto ha sido y está siendo uno de los más afectados por la crisis de la covid hemeretzi la movilidad internacional ha estado absolutamente parada y

lo que dice el propio sector que no va a recuperar más o menos la situación previa a la covid hasta al menos dos mil veinticuatro nos queda un camino importante por recorrer y desde luego

de ello en este caso bueno cuál es el trabajo que hemos hecho con todo este

nos hemos focalizado mucho pero no únicamente en la venta

bueno el principal objetivo del departamento ha sido el de garantizar que se desarrolle adecuado para mantener como usted decía no solo sede social y fiscal sino un proyecto consolidado y de futuro aquí en euskadi por tanto

en euskadi y qué significa eso bueno que permita superar estas consecuencias de esta crisis que ha sido muy profunda en el sector aeronáutico más que quizá en otros ámbitos pero que nos garantice

y además manteniendo y si es posible mejorando el posicionamiento de todo el sector aeronáutico y también de itp en la salida de la crisis

las oportunidades que se deriven de las grandes transiciones que se están trabajando

también esos recursos europeos lleguen a este tipo de actuaciones no hay que olvidar que en el sector del transporte aéreo tenemos mucho camino que recorrer en el tema de la descarbonización

vasco es decir que no solamente en ese proceso de compraventa se tenga en cuenta quiénes son los accionistas sino que exista garantía de empleo en la propia itp y garantía de trabajo con proveedores también

continuar trabajando en todo el sector han sido meses de reuniones de horas de conversación tanto con el gobierno del estado

con los accionistas posibles que han sido más de uno a lo largo del tiempo para mostrar dos cosas muy claras

pero basado en unos principios de arraigo sí pero de empleo de personas que existen en este momento en la propia empresa

dos premisas que han estado sobre la mesa de forma constante

a lo largo de todo el proceso ha habido conversaciones de diferentes niveles

inicial que todavía se tiene que ratificar hasta mayo de dos mil veintidós entre rolls royce y el fondo de inversiones bain para la compra

ya indicamos que la operación final se encontraba en sintonía con las condiciones que se habían establecido por parte del gobierno vasco

del empleo no podemos por tanto poner en riesgo la actuación

la empresa itp y ha habido momentos difíciles y no se lo oculto

no en el proceso de venta sino en el cómo se iba a realizar y

principales eso no significa que el resultado sea el mejor ni sea el óptimo pero es un escenario posibilista que nos permite continuar trabajando precisamente en ese proyecto de futuro y en el empleo de los trabajadores y trabajadoras para el gobierno las premisas que se habían establecido en este proceso de compraventa

en la aeronáutica en el sector aeronáutico vasco que su centro de decisión su domicilio fiscal y su domicilio social permanecieran en euskadi

con apuesta por el empleo y un proyecto que consolide la actividad desde aquí desde euskadi no quiere decir

que tengan como base las plantas en euskadi y pedíamos además medidas que garantizaran el control de esas actuaciones y para garantizar

nuestra posible presencia en el accionariado la parte cuantitativa de lo que va a suponer esa presencia además de eso lo importante desde luego es fijar esos mecanismos de garantía para que todos los requisitos establecidos se cumplan qué queremos decir con eso

una vez que se ha hecho vamos a decir ese acuerdo inicial en septiembre todo eso se ha de

gracias por la respuesta señora tapia la verdad que a nosotros nos faltarían mucho detalles sobre la pregunta que le hacemos y la pregunta que le hemos hecho

los requisitos que van a poner los mecanismos para que se cumplan esas cuestiones pero usted habla

y cuando ha hablado de las premisas que ustedes plantean para llevar a cabo esta operación

ha hecho referencia a quienes ya están en el grupo que es por donde yo he ido en mi pregunta pero no por una cuestión casual ni porque me gusta hablar de mi libro o de los conflictos laborales

sus condiciones y usted ha hecho referencia a ella es el mantenimiento del empleo

a quienes ya están desde luego nos sorprende nos contrasta que ustedes expliciten esto aquí y a la vez no sean capaces

de pcb que tienen una espada de damocles sobre ellos a pesar de las sentencias judiciales a favor y les están solicitando que claramente digan que la empresa

a los trabajadores que los tiene en casa a pesar de la sentencia a sus puestos de trabajo porque eso es mantenimiento del empleo entonces desde el punto de vista de las y los trabajadores y desde luego desde el punto de vista de una coalición como la nuestra se hace difícil tener la confianza suficiente

va a poner las garantías suficientes para que el mantenimiento del empleo en esta operación

cuando no son capaces de manifestarse en favor de estas trabajadoras y trabajadores que ya están en el grupo y cuyos empleos podrían estar en riesgo y que estamos viendo a la empresa que de manera descarada

con su intención de destruir este empleo eso es

y de los conflictos laborales nos parece que sería necesario yo sé que usted también me puede hablar de que a veces es necesaria la discreción yo no sé si cuando han hablado

con diferentes posibles accionistas han hablado de estas cuestiones yo no sé si le han trasladado a los directivos

o de pcb esta cuestión en privado pero creo que sería público y notorio y bueno para esta operación

abiertamente y dijeran claramente que en estos momentos no procede que pcb siga adelante con sus intenciones de destruir este empleo de dejar en la calle a estas ochenta y tres personas no procede

a favor de los trabajadores y no procede porque el gobierno vasco está interesado y está en una operación de entrada con capital público en la empresa

que es de interés general y además coincide con el planteamiento que hace usted misma mantenimiento del empleo y nos parece como le decía antes

para que grupos de la oposición como el nuestro pudiera confiar en que se va a hacer

de esa manera con ese requisito del mantenimiento del empleo en este caso en la empresa pcb por eso yo aprovechando la pregunta y por eso lo relacionaba

que se posicionen a este respecto creo que no pondría en riesgo para nada la operación y creo que usted es consciente de ello pero sí daría una confianza importante

nos llevaría a tener una mayor confianza en la acción de este gobierno a la hora de invertir en empresas públicas porque nosotros somos partidarios como le he dicho antes de la inversión

que no son solo los que usted plantea nosotros pensamos que la importancia de tener capacidad en la toma de decisiones es fundamental para todos esos objetivos que usted ha planteado entre ellos el mantenimiento del empleo y le pedimos por lo tanto pues que se posicione a este respecto porque nos parece como decía que esa sería

esta operación comprometerse con el empleo que ya está que ya existe en el grupo y que parte del grupo pretende destruir en estos momentos eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señor hernández le estaba diciendo cuando he cumplido el tiempo que precisamente esas garantías de actuación se deben llevar a un pacto de accionistas

de poder adoptar una serie de decisiones acerca de temas muy concretos y muy relevantes desde luego desde el punto de vista del gobierno vasco y es ahí donde estamos trabajando sea cual sea la composición accionarial y así se lo hemos ido transmitiendo

y siempre demostrando y mostrando nuestra preferencia porque además de ese socio financiero

industriales que de verdad también ayuden a mantener esa actuación

que hemos puesto sobre la mesa concretamente el arraigo de la compañía en euskadi y la autonomía en la toma de decisiones en el caso de que exista un socio industrial que sea relevante que se tomen las decisiones desde aquí el mantenimiento de la confianza en el equipo existente en estos momentos en el equipo directivo sí pero también en la plantilla actual eso está de esa manera de alguna forma transmitido

la colaboración con la cadena de suministro con todo lo que el sector en su conjunto

en programas y proyectos de futuro que permitan el crecimiento de la compañía y para ello vamos a utilizar todas las herramientas que están en nuestra mano una de ellas es la posible participación en la toma de capital siempre y cuando ese pacto de accionistas recoja de forma fehaciente

de una forma clara y con capacidad de decisión por parte del gobierno vasco y esta ha sido y va a seguir siendo la aportación principal que vamos a hacer al futuro

una aportación que desde luego confío que también pueda tener efecto positivo en esas personas afectadas

que se ha visto judicializado que les han dado la razón y que en este momento requerimos que esa empresa continúe trabajando con las personas que tiene

no es la forma más adecuada de trabajar el tener que llegar a unos conflictos judicializados creemos que realmente una relación

vamos por tanto a tratar de que si desde luego entramos como socios en esa empresa se garanticen todos estos aspectos en el pacto de accionistas y que además

aspectos que denominamos innovación no tecnológica a los que en muchas ocasiones no se les da tanta importancia como la tecnológica pero que en casos como este un modelo de gestión diferente

en cuanto a las formas de trabajo a futuro vamos a tratar de que esos dos aspectos se consideren de forma integral y que podamos

una de las empresas relevantes y tractoras en el sector aeronáutico vasco

parlamentarios mire en la parte expositiva de mi pregunta yo

por ejemplo que cuando salió este verano la noticia en etb sobre la retirada de una red en el seno de pasajes resulta que lo único que nos preocupó es el chaleco de la periodista que daba la noticia qué fuera aquello de preocuparnos por el medio ambiente a algunos parece que solo nos preocupa el medio ambiente terrestre lo verde de la fauna y la flora de nuestros montes pero qué hay de nuestro territorio bajo el mar

más allá de la encomienda en el año dos mil diez de un informe de oceana que estudiaba la fauna y la flora de nuestros fondos marinos nada de nada y oiga es importante que el sector para el sector pesquero defender las especies que se crían en nuestra costa y la pregunta es muy sencilla qué medidas de vigilancia y protección va a tomar su departamento para controlar y sancionar a quienes ensucian

señora muriel como usted decía desde luego en estos momentos es un problema de carácter de graves impactos y que la tipología de los residuos que nos encontramos de las basuras marinas son de diversas características orígenes tamaños composición y demás

son de carácter plástico los residuos que se acumulan

marinos por tanto tenemos que tener en cuenta que provienen

del dieciséis por ciento proviene de pesca y otro ochenta y cuatro por ciento tiene otro tipo de orígenes que están en tierra y probablemente proceden de nuestras costumbres y nuestros usos si lo analizamos también

nuestra costa nos podemos dar cuenta además que dadas las corrientes marinas que tenemos tenemos un poquito mayor que la media la

a través de medidas en primer lugar de análisis y desde luego de medidas de actuación qué estamos haciendo bueno

tanto desde el punto de vista de la contaminación marina en fondo como en la zona de ribera con especial atención a las microplásticos

minimizar la presencia de basuras marinas atacando desde dos puntos de vista desde la costa como decíamos con el ámbito pesquero y desde el mar utilizar todo eso que recojamos desde el punto de vista de la ecoinnovación y la reutilización de esos plásticos y que los podamos volver a introducir cadena de suministro trabajando de una forma especial con el área de puertos también del propio gobierno vasco inicialmente al menos tratando de reutilizar

tierra tratemos de evitar el que se produzca contaminación adicional por tanto continuamos además con iniciativas de recogida de basuras y demás pero creemos que en la prevención está la mayor parte de nuestra

tenemos un entorno privilegiado bajo el fondo del mar y aquel informe que le he mencionado antes el de oceana

en peligro y varias especies vulnerables en nuestros fondos sería interesante volver a retomar aquella situación para ver cuál ha sido

y un nuevo informe de esas características lo que haría sería darnos una lectura

para preservarla y que además lo voy a decir una cosa con las experiencias que han surgido

de la península sabemos perfectamente que la protección de esos medios

que mejora muchísimo la pesca en esos lugares por lo tanto creo que deberíamos de ir más allá y tendríamos que hacer

más apuestas aparte de lo que es la concienciación y el no vertido a los mares desde la costa es muy importante qué hacemos para proteger el medio marino

señora muriel estoy de acuerdo que no solamente tenemos que actuar

cómo afecta a la pesca pero no solo a la pesca sino a todo el conjunto de la fauna que tenemos en el medio marino y de ahí nuestra colaboración estrecha

lo que está ocurriendo y que nos ayuda realmente a adoptar medidas en el sentido de gestionar y de reducir los residuos que estamos llevando al mar sea por la pesca pero también sea por lo que estamos actuando desde tierra tenemos que evitar esa llegada de los residuos al mar haciendo un análisis constante de qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la cantidad de residuos que existen pero a su afección también

pero creo que contamos con el mejor colaborador y desde luego en ese sentido continuaremos trabajando no solamente con ellos sino también con las propias diputaciones forales con una agencia como ura que es muy relevante en cuanto a la limpieza por ejemplo del cauce de los ríos de tal manera que no se lleve el plástico que existe en los ríos y la basura que existe en los ríos al mar sino que tratemos de evitarla previamente nos queda un trabajo largo por hacer pero creo que puede ser el camino adecuado

la de consultas previas se ha publicado la resolución de inicio hemos hecho una primera fase de la participación ciudadana elaborando un documento base donde se presentan objetivos alcance metodologías y se pretende continuar con la tramitación se ha presentado el documento base a diversos grupos y agentes sociales

cuarenta y siete diferentes agentes representados en ciento nueve personas con entidades y departamentos asociados al gobierno vasco el sector asociativo medioambiental y social diputaciones forales eudel organizaciones empresariales y sindicales empresas del sector energético vasco universidad

ayuntamientos bueno creo que se ha hecho un proceso importante que junto con tres focus group uno por cada territorio con representación de la ciudadanía

un documento con todas las aportaciones que nos permita abordar el avance del plan estratégico y abordar la segunda fase de lo que va a ser este plan esta segunda fase requiere la evaluación de impacto ambiental como usted conoce a las administraciones públicas territoriales un segundo proceso de participación ciudadana y esperamos que en dos meses y medio tres pueda estar finalizado

durará un tiempo pero creemos que vamos en la dirección

pero ya se ha realizado la primera fase y creemos que con una participación y escucha activa bastante intensa eskerrik asko

para quien no sabe a qué puerto se dirige y me da la sensación que nos puede estar pasando esto porque creo que

arkamu iturrieta labraza azazeta orain azazeta bigarrena

y cuándo y por qué porque hay informes del gobierno vasco que hablen de la incompatibilidad con la conservación del medio

sobre el anuncio del segundo parque en azazeta se une al proyecto anterior

supera los cincuenta megavatios entonces hay que empezar toda la tramitación otra vez en madrid o se van a tramitar por separado pero entonces tendríamos un problema tal vez de fraude de ley por fragmentación de proyectos

gure lurralderako ezta vemos algo de renuncia

donde sí donde no cuándo cuánto y que se actúe y en lugar de todo eso

el mercado y a veces con impulso público y además está actuando sobre todo sobre araba en el que hay sectores agrícola ganadero el mundo rural en general que está viendo que se le está viniendo un chaparrón encima ve con incertidumbre muchísimos movimientos muchos aleatorios a menudo que huelen bastante a especulación y no estamos consiguiendo nada más que generar una desconfianza

ante este proyecto de transición que estamos de acuerdo en que hay que hacer sí o sí ezta herritarren atxikimendua behar da baina iruditzen zaigu gauzak ez doazela batere ondo

esta es la tercera vez que nos vemos obligados a traer a esta cámara en esta legislatura el plan renove de automoción

y que ustedes prefirieron mirar hacia otro lado y votar en contra a pesar de que era evidente su necesidad la segunda vez porque pese a haber rechazado nuestra propuesta ustedes copiaron parte de ella y lo hicieron mal porque descartaron de las ayudas a los coches diesel y gasolina de calificación energética b y cien en contra

y hoy le volvemos a traer por tercera vez el tema porque el plan renove que ustedes han presentado a la vista de los datos podemos decir que no está sirviendo que no está siendo eficaz que no está funcionando y si la chapuza continúa me temo que tendremos que volver a hablar de este tema una cuarta vez son como ese mal estudiante

pero señora consejera aquí no hay una ley celaá

veamos los datos en mayo antes de su plan renove en euskadi se matricularon ciento noventa y tres vehículos electrificados frente a los ciento ochenta y seis que lo hicieron en septiembre

que su plan renove no ha supuesto un incentivo para la compra de vehículos electrificados

cómo valora usted el programa de ayuda a inversiones en vehículos eficientes y alternativos pavea dos mil veintiuno le parece a usted un éxito

el objetivo prioritario del programa de ayudas es incentivar la renovación del parque móvil de la comunidad autónoma

más eficientes y de combustibles alternativos es decir no es la renovación por la renovación

de ahondar en la transición energética y de conseguir menos emisiones de ce o dos de ahí que el programa de ayudas dotado con cinco millónes de euros desde luego

solamente califica y trabaja con vehículos eléctricos electrificados de gas o aquellos de calificación a no vamos a entrar en los de b y cien no es objetivo desde luego de renovar los vehículos para que sean más eficientes y con menos emisiones hasta el programa termina el treinta y uno de octubre de dos mil once y a fecha de once de octubre es decir a veinte días se habían recibido novecientos ochenta y seis solicitudes

ciento diecinueve resueltas positivamente y ciento sesenta y dos en estudio que probablemente serán positivas y la estimación del presupuesto comprometido es de un un millón setecientos cincuenta y cuatro mil euros menor de los cinco millónes de euros y está siendo muy diferente al del año dos mil veinte es cierto pero los requisitos son exactamente los mismos que los del dos mil veinte exactamente los mismos

y desde luego a la acción contra el cambio climático calificación energética a

le voy a señalar cuál es la razón por la cual se ha comportado de forma diferente el procedimiento europeo de homologación de consumos y emisiones de vehículos desde luego se estableció para que entrara en vigor en el año dos mil diecisiete sin embargo en el estado

luego esos vehículos de calificación a son menos que los que existían en el año dos mil veinte es cierto

suficientes y que hay una amplia gama de vehículos que cumplen con estas características y que se pueden adquirir ese es el objetivo que nos hemos planteado y desde luego

principal transición energética y menos emisiones de ce o dos

bueno lamento haberme quedado con las ganas de saber si incluso el objetivo de transición energética

pero en todo caso veamos los datos en mayo en euskadi se vendieron el dos coma noventa y dos por ciento de todos los vehículos electrificados de españa en septiembre esa cifra

de todos los vehículos electrificados de españa esto muestra una tendencia a la baja que este plan no ha sido capaz de mitigar por lo que si bien podemos decir que no estamos parados

bastante más rápido que nosotros y nos estamos quedando atrás

estamos de acuerdo en que son el futuro pero los vehículos diesel y gasolina son el presente son el presente de las más de cuarenta mil personas que trabajan en un sector compuesto por más de trescientos empresas

está haciendo mucho daño hasta el punto de que debido a la incompatibilidad de las ayudas a los vehículos eléctricos entre el plan renove vasco

iñigo ansola ha indicado que desviará las solicitudes de ayuda a vehículos eléctricos al plan moves

más beneficioso para los solicitantes de las ayudas si queremos reducir las emisiones

actuales incluyendo las tecnologías tradicionales ya que un vehículo de categoría energética cien es mucho menos contaminante que cualquier diesel de más de diez años que circula por nuestras calles no lo ve usted así señora consejera

no solamente hemos financiado vehículos electrificados sino otro tipo de vehículos y ahora se los voy a y bandazos precisamente ninguno el programa es exactamente igual que el del año dos mil veinte eso es lo que estamos buscando creo que lo compartirá usted o no pero lo que buscamos es lo que buscamos qué financiamos

ligeros eléctricos puros ligeros híbridos enchufables o eléctricos con autonomía extendida vehículos ligeros a gas natural

vehículos de gasolina o gasóleo de categoría eme uno con calificación energética a vehículos de gasolina o gasóleo de categoría ene uno

de gases de efecto invernadero inferiores a ciento catorce gramos de ce o dos por kilómetro

con emisiones inferiores a ciento ochenta y cuatro gramos perfectamente tasado y calificado eso es lo que estamos haciendo y el desvío

va en beneficio de la ciudadanía de las personas que menos recursos pueden tener que más les puede costar y por tanto hemos desviado esas solicitudes a las mayores ayudas de tal manera que los vehículos de gas de gasolina y los diesel los podamos financiar a través de estos programas pero siempre con esas características

posibilidad de intervención por parte del gobierno itp es una empresa donde la parte social ha ganado con la de ayer cinco sentencias antes decía que no hay que judicializar pues si no pueden judicializar no pueden hacer huelgas qué es lo que tienen que decir amén a los despidos cuando en este caso

eso en una empresa en la que están interesados en entrar el capital no les lleva

en analizar la función social de las empresas y qué prácticas empresariales se pueden aceptar o no

dirección irresponsable que ha mantenido con una actitud cerril un conflicto que ha puesto en peligro la propia pervivencia de la empresa y que además

y cuando usted antes hacía mención al capital humano en tubacex la dirección ha destrozado la convivencia de la empresa

ocho meses y mirar a otro lado en este caso es el que calla otorga y asintiendo unas prácticas absolutamente una mala praxis empresarial en tubacex y hay otros casos

no quiero abusar del error técnico pero decía que

restricciones temporales del empleo que ha quedado demostrado y digo demostrado porque no

del aumento de la carga de trabajo en esas empresas ha mostrado que eran ertes preventivos yo mando a la gente a casa por si acaso mientras tanto me ahorro un dinero y luego ya veremos lo que pasa no se puede jugar así con la gente tanto en petronor como aernnova las propias empresas están limitando

entonces estamos hablando no de todas las empresas no de todos los empresarios pero sí que en determinados momentos puntuales yo le pido le pregunto si aceptan como hipótesis de trabajo

que como gobierno estén en la obligación desde una postura institucional pero denunciar y de pedir que se corrijan

que no puede cerrar aquí una planta para luego llevársela a otro sitio se lo ha dicho lo ha dicho en contadísimas ocasiones en contadísimas y solo cuando ya

de lo que es humillación por tanto guk esan behar dugu hemen egon dira

ninguna respuesta negativa por parte del gobierno a cualquier tipo de mediación de trabajo conjunto de análisis por parte de ambos departamentos cada uno

y en ese sentido por parte del departamento que dirijo con los representantes de trabajadores y trabajadoras y con la dirección de la empresa siempre ponemos sobre la mesa tres actuaciones importantes

tres aspectos en los que hacemos especial hincapié en la necesidad de ahondar la interlocución

sentarse a hablar con vocación de buscar un acuerdo en la necesidad de explorar nuevas medidas todas las vías posibles para que en el caso extremo de tener que proceder a un ere sea no traumático siempre lo he dicho y en la puesta a disposición

la última de ellas la intermediación por parte de trabajo y empleo para que eso sea una realidad y señor casanova como decía una persona muy importante de nuestro partido el que calla calla

buenos días de nuevo a todos consejera consejero señorías bien

especializadas del ámbito sanitario vimos hace poco que el gobierno de españa y las comunidades autónomas habían acordado fue hace quince días más o menos aprobar algo

un plan de acción específico sobre atención primaria antes de que termine el año y esto anunciado en el marco de encuentro de atención primaria retos y oportunidades

que se aprobó por según decían los medios de comunicación por mayoría y el análisis es importante ese encuentro de las comunidades autónomas

para hablar de atención primaria yo creo que es algo importante y que valorarlo como tal y en el momento nosotros que vimos que los consejeros de salud y sanidad se habían

encuentro de atención primaria en canarias quisimos saber lo que se acordó lo que se habló lo que se decidió y en concreto lo que

de la sanidad vasca vuelvo a decir estamos hablando todos en todo momento de reforzamiento de la atención primaria

por lo menos en ese sentido a otro nivel no autonómico sino a nivel interterritorial

medidas y decisiones y sobre todo porque se habló

de atención primaria de dos cuestiones decididamente importantes del reforzar como concepto la atención primaria en líneas generales y también de lo que tendría que ser esa coordinación

y además no solamente la interinstitucional o administrativa sino con las organizaciones profesionales científicas sociales

cuestiones son importantes y se ha puesto un plazo

que es antes de que termine este año presentar un plan de acción específico sobre atención primaria es posible que ahí estará la valoración usted algo nos dirá es posible que ese tiempo sea poco tiempo a algunos les parece mucho tiempo y que ya debería

habrán tenido o tendrán y que lo que será bueno es que redunde en medidas concretas de reforzamiento de la atención primaria pero bueno lo fundamental será

en todos los ámbitos posibles efectivamente las comunidades autónomas

en sanidad en atención primaria pero sí que el reforzamiento a mí me pareció ver ese nivel a nivel

se hacía también dentro del consejo interterritorial y con eso mismo se verían más posibilidades de fortalecer la

en otro ámbito en ese ámbito interterritorial como comentábamos está bien claro y eso lo vimos también en las informaciones especializadas y también

en la página del ministerio lo que se había hablado la declaración estaba orientada a un abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes la práctica clínica centrada en la persona y la comunidad

la mejora de la capacidad de resolución diagnóstica fortalecimiento de la

longitudinalidad de la atención que tendría en cuenta también

el crecimiento profesional el impulso de los sistemas de información la digitalización

del fomento de la innovación y de la investigación la adaptación y formación de los recursos humanos garantizando la efectividad sostenibilidad la calidad de la atención primaria

en esta cámara también decía que los firmantes se comprometen a adecuar la política presupuestaria

desarrollo normativo que posibilite la consecución de los objetivos del plan de acción trabajar de forma específica en el pleno de la comisión de recursos humanos

estamos representados a través de las personas del departamento de salud del gobierno vasco

de la formación sanitaria especializada en la atención primaria de salud cuestiones básicas cuestiones muy relevantes como he dicho antes dentro de los conceptos que todos hablamos del reforzamiento de esa parte asistencial y mediante esa declaración también se instaba a las organizaciones profesionales sociales

con el fin de trabajar en conjunto porque son esenciales para el fortalecimiento de esa atención se dijo que

para seguir mejorando y el cuidado de la salud de la ciudadanía es una obviedad está claro pero bueno

y hay que hacerlo también se puso de relieve en la declaración de

el trabajo en equipo y por competencias en la atención primaria proporciona las mejores respuestas a los problemas de salud mejora la experiencia individual de atención garantiza la equidad

donde nosotros nos integramos refuerza la cultura del cuidado etcétera en definitiva un sistema resiliente capaz de dar respuesta ante la eventual crisis sanitarias

propuestas concretas es una declaración y como tal hay que tomarla porque todo esto se tiene que traducir

que en medidas concretas también lógicamente hubo un reconocimiento a la atención primaria en españa

tenemos que reiterar ese reconocimiento a la atención primaria también en euskadi como una de las señas de identidad del sistema nacional de salud y del sistema vasco de salud efectivamente y la mención al impacto de la covid diecinueve estuvo como elemento fundamental también en esa clave de reforzamiento de la atención primaria yo concluyo porque son cosas muy importantes o muy interesantes en ese encuentro participó nuestra consejera de salud y en ese sentido a la vista de este trabajo que hay que hacer porque es un trabajo supongo en el que se coordinarán y se colaborará le preguntamos a la señora

en la confección del plan de acción sobre atención primaria anunciado por la ministra de sanidad

me interpela señor barrio sobre cuáles son los propósitos del gobierno vasco en relación al plan de acción sobre atención primaria publicitado por el ministerio de sanidad

los mismos criterios que hemos mantenido siempre primero cumplir y hacer cumplir nuestras competencias en materia de atención sanitaria y promoción de la salud y segundo colaborar con el resto de las instituciones en todas aquellas materias que respetando nuestra competencia ayuden a mejorar la salud de la ciudadanía es verdad los pasados treinta de septiembre y uno de octubre participamos

promovido por el ministerio de sanidad en el seno del consejo interterritorial de salud

una puesta en común sobre la visión que cada comunidad y ciudad autónoma tiene sobre los problemas y retos a los que se enfrenta la atención primaria

entre las diversas materias expuestas hay un diagnóstico que es común la escasez de profesionales de medicina especializados en atención

no cabe ninguna duda de que la atención primaria es el eslabón básico de la promoción y defensa de la salud y de la atención sanitaria y sin embargo tenemos serias dificultades para encontrar relevos para el personal que trabaja en ella y la causa de este problema

ni al resto de comunidades autónomas tampoco al actual ministerio de salud

de que la planificación de las convocatorias para la formación de determinadas especialidades no contempló en su día el relevo generacional que se avecinaba con la jubilación de muchos y muchas de nuestras facultativas esta situación se va a prolongar durante un tiempo y es difícil de cuantificar

porque no sabemos a qué edad se van a jubilar las personas que alcanzan los sesenta y cinco años sabe bien que si lo desean pueden seguir adelante con sus carreras durante varios años más tampoco sabemos si quienes están haciendo su especialización en euskadi y son de otras comunidades se quedarán

y en sensu contrario personas de euskadi que están haciendo la especialidad fuera de nuestra comunidad puedan volver una vez finalizada la misma

las dificultades de una planificación adecuada al respecto luego la segunda jornada la segunda jornada estuvo dedicada íntegramente

en torno a una declaración que imagino que ya conoce nosotros no

del ministerio de sanidad y nosotros nos abstuvimos

declaración que reconoce lo que ya venimos nosotros diciendo que la atención primaria continúa siendo una de las señas de identidad del sistema de salud se reconoce

un obstáculo importante para implantar nuevas acciones en este ámbito pero también ha puesto en valor la lucha contra el co virus contra la covid diecinueve y el papel

entre otras tareas saben bien que ha asumido el diagnóstico tratamiento y seguimiento de casos leves y moderados de covid diecinueve y ha sido clave sin duda la campaña de vacunación

constata la necesidad de revisar el actual modelo de atención primaria teniendo en cuenta la experiencia acumulada en las dos últimas décadas y singularmente la vivida durante la pandemia provocada por la covid hemeretzi el acuerdo en su primer punto

un plan de acción antes de que finalice el año veintiuno con la convergencia de iniciativas que ya han puesto en marcha las comunidades autónomas así como las nuevas que puedan surgir en el proceso de elaboración del plan el segundo incluye la orientación que se quiere dar

de los problemas de salud más frecuentes la práctica clínica centrada en la persona y la comunidad considerando los determinantes sociales de la salud la mejora de la capacidad de resolución diagnóstica el fortalecimiento

el crecimiento profesional el impulso de los sistemas de información y la digitalización

de la innovación y de la investigación la adaptación y formación de los recursos humanos garantizando la efectividad la sostenibilidad y la calidad de la atención primaria el tercer punto de la declaración habla de adecuar la política presupuestaria

el cuarto punto es un compromiso a trabajar de forma específica en la actuación actualización y adaptación de la formación sanitaria especializada de la atención primaria y el quinto efectivamente que usted sí ha mencionado invita a las organizaciones profesionales pero en ese punto científicas sociales y políticas a adherirse a la declaración

y la razón es la misma que nos ha llevado a abstenernos durante estos últimos meses en otras votaciones

la intromisión en temas que consideramos de nuestra competencia exclusiva euskadi tiene experiencia en la gestión sanitaria en la atención primaria

en cualquier foro en el que se solicite nuestra colaboración o participación a este respecto no tengan ninguna duda siempre colaboramos y lo seguiremos haciendo compartimos la reflexión sobre la importancia de la atención primaria sobre la evaluación y renovación constante

y compartiremos nuestra experiencia lo que no podemos compartir es que el plan de acción se adentre en materias que nos corresponden por competencia exclusiva y se las voy a citar práctica clínica

diagnóstica crecimiento profesional sistemas de información y digitalización fomento de la innovación y de la investigación adaptación y formación de los recursos humanos compromisos

todo esto entra dentro del ámbito de nuestra competencia

a quien le corresponde desarrollar no negamos la colaboración y la participación

en el respeto de nuestras responsabilidades eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea barrio jauna zurea da hitza

señora consejera por las explicaciones y por la información en relación con lo fue ese encuentro del que teníamos una

medios de comunicación pero me da un poco de

porque la actitud abstencionista

en este caso de reforzamiento de la atención primaria lo tenemos que enfocar como una prioridad una prioridad esencial de nuestro sistema

ámbitos de colaboración o de interactuación el consejo interterritorial y esa

hay una determinada desconfianza desconfianza en esos objetivos usted ha leído los objetivos yo antes también he visto por dónde iba y yo supongo que como el país vasco en nuestras competencias las demás comunidades autónomas tienen las mismas en este tema y supongo que habrá una posibilidad de orquestar de llevar en este caso pues la batuta le correspondería al ministerio de sanidad pero una actuación común chocase contra las competencias de las comunidades autónomas pero que sí fuese reforzadora de diferentes ámbitos supraterritoriales o interterritoriales

que será en ese marco y en ese plan donde se puedan superar las limitaciones o las deficiencias que usted ha puesto

de manifiesto y que están ahí en relación con la escasez de profesionales y con la necesidad de nuevos profesionales

y que se podrá hablar de eso o sea que sea el plan de acción facilitador de actuaciones no

tiene que gestionar y tiene que liderar en el departamento de salud y en relación con el reforzamiento de la atención primaria que eso también lo hemos hablado aquí es un mandato también parlamentario

con otras sinergias que son las que dependen del ámbito y del consejo interterritorial del sistema nacional de salud en el que ustedes

con una actitud por lo que veo bastante abstencionista pero bueno pero en cualquier caso en la medida que apliquemos todos

la atención primaria yo creo que nos tenemos que mover más igual en el ámbito de la confianza

y por eso sí que me gustaría saber que

porque habrá materias en las que se puede actuar en conjunto o sea que no son solamente privativas o que lo son pero que salen reforzadas de actuaciones conjuntas también en este tema

a pesar de la actitud de abstención en relación con el plan

de acción del anunciado por la ministra si usted va a aportar si usted va a mandar a los grupos de trabajo personas o profesionales o directivos de osakidetza o de la sanidad pública para construir ese plan

o para hablar también de las cuestiones que ven negativas o que ven que

si se va a ser proactivo por parte de su departamento si participará en los grupos de trabajo antes hemos hablado de que el grupo de trabajo más importante o por lo menos el ámbito más

de recursos humanos del consejo interterritorial del sistema nacional de salud precisamente para esas cuestiones de formación sanitaria especializada participarán yo supongo que esta actitud hará que participen

parece ser que ese ámbito será en el que podamos desarrollar y superar esas dificultades o sea que yo está claro que si hay ese ámbito supracomunitario de reforzar la atención primaria y podemos beneficiarnos

tendremos que apoyarlo nosotros bueno después de la interpelación y de escucharle a usted en la réplica creo que

en el seno del consejo interterritorial en el fortalecimiento de la atención primaria

estamos pendientes de su segunda intervención muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio creo que no me ha entendido en mi primera intervención que la reflexión de la atención primaria claro que coincidimos y claro que podemos hablar

desde luego lo que defendemos es nuestra competencia que es lo que hicimos con esa abstención y participamos

participamos y además que nosotros la reflexión sobre la atención primaria la tenemos hecha

en este parlamento porque de hecho euskadi ese camino lo tiene iniciado incluso con algunas etapas cumplidas que no tenemos

en la elaboración del documento marco estratégico para la atención primaria y comunitaria

del dos mil diecinueve en el seno del consejo interterritorial de salud y que en muchas

de sus redacciones podrá usted identificar la estrategia de atención primaria de euskadi en segundo lugar

una estrategia para la atención primaria destinada a dar respuesta a los retos que hacía referencia como digo tenemos la propia y además la tenemos iniciada que además le recuerdo porque estoy segura de que la conoce se resumen en siete líneas y treinta y cinco acciones concretas todas ellas puestas en marcha las líneas estratégicas son revalorización

adecuar la estructura de los equipos de atención primaria a los retos demográficos y epidemiológicos optimizar la organización y gestión de los equipos de atención primaria profundizar en el despliegue del perfil de la enfermería evitar

consolidar el modelo de atención pediátrica en atención primaria aplicar en la atención primaria los planes de normalización lingüística y de igualdad de género y lo voy a señalar solo las acciones más destacables que como le digo están en marcha una

en los centros de atención primaria con mayor carga asistencial y refuerzo de enfermería en algunos cupos ligados a la pediatría

de los sistemas tecnológicos este último año hemos abierto tres centros de salud en bilbao donostia y murgia

llevamos gastados catorce millónes este año desburocratizar la labor del personal médico y de enfermería para que pueda dedicar el mayor tiempo posible

con el fin de evitar desplazamientos al hospital para solicitar pruebas

sean más resolutivos modificar el modelo de agenda para racionalizar el número de pacientes que se visitan por día y para reducir las demoras potenciar el papel de la enfermería con la puesta en marcha de consultas de enfermería tanto en el centro de salud como en la atención a domicilio o comunitaria

ayudando a reducir las demoras reforzar la atención primaria integrando la fisioterapia en su cartera de servicios esta es nuestra realidad señor barrio esto es lo que ya estamos haciendo en la atención primaria no solo reflexionando eskerrik asko

problemas de salud mental en una juventud señalada y precarizada

como nunca tras la pandemia la pandemia aumenta un cincuenta por ciento los adolescentes hospitalizados por salud mental la ola de anorexia e intentos de suicidio entre los adolescentes sigue en aumento

en euskadi la covid dispara los trastornos alimentarios en gipuzkoa los adolescentes

pero no se llega a atender la salud mental de la ciudadanía entendida de una manera integral y entendida como el bienestar general de un individuo capaz de afrontar las presiones normales de la vida

desde el bienestar y no entendiendo únicamente como la ausencia de enfermedad

porque todas entendemos que si yo sufro una caída me caigo una rotura un esguince lo que sea me acercaré a mi ambulatorio o

el sistema debe atender cuando yo tengo una necesidad física puntual también si sufro una enfermedad de más largo recorrido o una crónica

idas y venidas de la vida por una pérdida por un duelo por una situación complicada a nivel relacional laboral o equis

porque me encuentro mal anímicamente porque he tenido una o varias crisis de ansiedad porque siento tristeza y esto no me deja desarrollar mi vida con normalidad y plenitud

si esto se alarga en el tiempo y no tengo mecanismos suficientes para afrontarlo pues seguramente me acerque a mi ambulatorio y allí me daría cuenta de que mi médico mi médica mi enfermera de referencia

entre cinco y diez minutos de media dependiendo del centro y eso se lo puede decir cualquier administrativo de osakidetza que en este momento esté dando citas en atención primaria

nos vale pero para hacer un análisis en profundidad de cómo está un paciente a nivel emocional nos hace falta más tiempo y no pongo en duda eh que los profesionales de osakidetza no dediquen a cada paciente todo el tiempo que necesita

o no sé cómo se apañan pero lo hacen pero que vaya también aprovecho por delante

y sin pandemia pero partimos de que no tienen suficiente tiempo para atender a las personas y que además no me va a ver un profesional especializado en salud mental y seguramente me ofrezcan algún tipo de medicamento y me digan bueno te vamos a dar esto

intenta bueno tómatelo si tienes un momento de necesidad y si ves que la situación sigue así

a un centro de salud mental si es que ocurre porque no siempre ocurre y si ocurre

una profesional un profesional de la salud mental pero bueno que también ocurre que

de primaria a salud mental luego vuelven a primaria y

me daré cuenta de que el sistema no me puede dar una terapia unas sesiones continuadas en este momento en el que yo he necesitado una ayuda profesional un apoyo profesional

que ojo la red privada también está saturada por el impacto de la pandemia

y hay una realidad y es que no llegamos a atender la salud mental como atendemos el resto del espectro de la salud

hasta dónde estás dispuesta a llegar hasta dónde está usted dispuesta usted a llegar qué está dispuesta a hacer

los medios la importancia que se merece y la respuesta eskerrik asko eskerrik asko garde andrea sagardui andrea zurea da hitza

en muchas personas por las medidas de control de la actividad y la movilidad durante la pandemia no puede considerarse de la misma manera la expresión de ese malestar

no tiene que ser sistemáticamente recogido por el sistema sanitario la sociedad está conformada por personas

en diferentes situaciones vitales relacionadas con experiencias traumáticas o de pérdida

especialmente en nuestra cultura que están relacionados con las redes sociales y familiares en las cuales podemos encontrar si no solución sí alivio al malestar psicológico asociado a la experiencia adversa

siempre hay una cobertura del sistema sanitario a través de la atención primaria o cuando se requiere incluso en las redes de salud mental en las cuales encontraremos atención

sin subestimar el impacto que ha tenido la pandemia en sus elementos más traumáticos como el confinamiento la soledad no deseada el estrés y el impacto económico de la población en general

hay que destacar también que en términos generales la capacidad adaptativa de la sociedad ha sido elevada y también que los recursos puestos desde los servicios públicos para el apoyo y gestión de dicho malestar han sido constantes

sin fecha pero bueno entiendo que es en el contexto de pandemia porque es la revisión de la situación de la atención psiquiátrica a niños y adolescentes

desarrollado pero es que se dice que las medidas adoptadas se han visto desbordados

y se hacen necesarios otros planteamientos seguramente esta situación es estructural se dice y la pandemia covid ha actuado como desencadenante y aquí en este informe aparecen

hau da en resumen antes de la pandemia faltaban estructuras la pandemia nos ha superado no teníamos recursos para atender todo esto

gipuzkoa ha realizado un estudio en torno al suicidio en la provincia y dos cosas que se han salido de este estudio que para mí son relevantes la primera que la mayoría de esas personas que se suicidan ocho de cada diez

es decir las personas que están en situación de sufrimiento buscan ayuda profesional en el sistema se acercan a nosotras buscando

para mejorar nuestra estrategia de atención y prevención del suicidio y la segunda es que la mayoría de aquellas personas se acercaban a atención primaria ahí está la clave en la atención primaria y al margen de este estudio los suicidios si hablamos de atención mental

entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de las consultas que llegan a la red de salud mental llegan desde primaria entiendo que el otro

y entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de las intervenciones que se hacen en primaria tienen que ver con la salud mental de la ciudadanía

y más allá del que no podemos gestionar por nosotras mismas y que sí que necesita apoyos profesionales

es el sitio de proximidad de forma natural al que nos acercaríamos todas pero claro lo hemos dicho antes la primaria y se ha hablado en el debate anterior en la intervención anterior el pilar fundamental de nuestro sistema y entrada al sistema está desbordada como está

y es una pena porque con más profesionales y

no de sacar equipos de salud mental y derivarlos a primaria no de nuevos equipos en primaria de salud mental

más prevención y promoción de la salud mental terapias grupales por ejemplo para tratar esas ansiedades y estrés y depresiones que son las casuísticas

trabajar en red con los centros educativos con los servicios sociales de base

más aún tenemos analizadas las obras de otro recurso de la red de salud mental de bizkaia ha destinado a ofrecer asistencia en salud mental

o con alto riesgo psicopatológico y social en un contexto comunitario evitando las hospitalizaciones eta hauek egia dira bai garde andrea donostiakoa bada

en este caso en el último que les digo que estamos para abrir en bizkaia los objetivos son entre otros el intervenir

y las adolescentes para lograr su reincorporación al medio escolar y social detectar precozmente e intervenir en los casos de absentismo escolar

y coordinar con servicios educativos y sociales para mantener la continuidad de cuidados

en las urgencias del hospital de donostia y de basurto y se están gestionando la incorporación de esa figura también en las urgencias de los hospitales de santiago txagorritxu y cruces egia da ez ezetzik esan

y sin salir del ámbito hospitalario se está gestionando la creación de dos hospitales de día vinculados al hospital de galdakao para adolescentes uno relacionado con los trastornos de conducta alimentaria y otro para jóvenes con adicciones

profesionales de la psiquiatría especialmente en aquellos de psiquiatría infantil por la falta de profesionales formados pero no me digan que sí porque eso no entra en la voluntad de osakidetza y lo he explicado anteriormente sino la falta de previsión

a la hora de crear los y las profesionales garde andrea ez ditzagun gauzak nahastu ez horrelakoetan zahartu mesedez y finalmente desde el año pasado

contempla diferentes niveles de actuación apoyo a trabajadores que tienen como objetivo prevenir y atender

apoyo a los propios pacientes y a familias de pacientes hospitalizados y apoyo a la ciudadanía en general a través de diversos instrumentos también

y finalmente se ha desarrollado también en coordinación con la atención primaria en coordinación con atención primaria con los centros de salud mental y con los servicios hospitalarios actividades de seguimiento de enfermos y enfermas mentales en su domicilio uste dut hitzez hitz erantzuna eman diedala

eguerdi on eskerrik asko legebiltzarburu andrea vivimos pensando que había sido eta hasta que salió lo del juicio que implicaba a

hay víctimas de primera de segunda y de tercera

la madre de josé antonio cardosa morales no sé no cree que estas palabras el dolor que estas palabras transmiten merecían una pronta respuesta

honako hau erantzun du lo que pasa es claro tienes que pasar por alto y aunque te revuelve la conciencia hay que defender el estado hay que defender

estali nahi delako porque precisamente esa va a ser la versión oficial el gobierno

en aquel momento dijo que las cartas bomba tienen sello de eta

para no asumir ningún tipo de responsabilidad el pse aquí también enarboló bandera falsa

será una campaña manipuladora de hb y dando precisamente la responsabilidad o poniendo la responsabilidad sobre sus objetivos y el pnv guardó

uno cuál es la verdad vivimos pensando que había sido eta concha morales joxean cardosaren ama

puede que esté en los papeles y de vez en cuando se encuentra en esos documentos que siguen todavía clasificados bajo una ley

para esas víctimas saber la verdad es crucial es importantísimo y cuando surge un rayo de luz debemos de acogerlo debemos de darle fe debemos darle credibilidad y visibilidad lo poco a lo que estas víctimas se siguen aferrando y es la institución pública quien debe hacer este papel lo que pasa es que hasta ahora al menos la institución ha estado callada las víctimas en este caso me temo que se han encontrado con una consigna de silencio que ha sido atronador un silencio que ha sido doloroso ante hechos de terrorismo

se han encubierto con fondos públicos desde las estructuras públicas su socio de gobierno señora artolazabal se ha expresado en esta misma cámara

si se demuestra y este condicional es el que marca la diferencia porque ese es el problema

toda evidencia ha sido borrada por un estado que se autoencubre con eficacia el último hecho de autoencubrimiento

para explicar estos hechos si se demuestra se dice mientras se cierra puerta a cualquier iniciativa para poder demostrarlo es esa la hipocresía a la que nos estamos enfrentando bi zer

hiru zer egiten ari gara biktima hauen erreparazioaren alde hay víctimas de primera de segunda y de tercera berriro

mencionaba intxaurrondo sí y porque ha sido como otros tantos acuartelamientos y comisarías un centro en el cual se ha practicado la celebración del día de la hispanidad el doce de octubre recientemente y donde se ha dado homenaje y loas a la guardia civil por sus servicios prestados

a la guardia civil por su compromiso lealtad y servicio y agradeció a todos y cada uno de los agentes la excelente labor realizada en esos tiempos tan difíciles no especificó si incluía también la labor prestada cuando se practicó la tortura

si su compromiso y servicio consistía en ejecutar extrajudicialmente a ciudadanos vascos por medio de la bañera

hoy treinta y ocho aniversario de la desaparición de

o con paquetes bomba como en el caso de josean cardosa ninguna autocrítica por parte del delegado del gobierno

sin duda era la de otros aquí mismo en este mismo parlamento se dijo que efectivamente eran días de homenaje y la guardia civil lo merecían y merecían ser tratados como héroes como vencedores porque enfrente están las vencidas todas esas víctimas

para conseguir un ápice de verdad de justicia de reparación víctimas del estado

el sentimiento de humillación que les producen estos homenajes que suponen según sus propias palabras la exaltación de la violencia que vulneró nuestros derechos humanos

ondo iruditzen zaizu si estos actos anuales son aportación a la convivencia en este país si usted acoge también

de estas víctimas y se hace eco de su dolor vivimos pensando que había sido eta

hasta que salió lo del juicio que implicaba a los políticos del psoe

ez zuten inolaz ere justizia jaso hay víctimas de primera justizia jasotzen dutenak de segunda egia lortzen dutenak y de tercera erreparazioa

mila esker zure galderagatik señor arzuaga más allá de las informaciones publicadas por un medio de comunicación estatal desconocemos nuevos detalles en relación con estas revelaciones lo que sí yo le puedo decir es que estas acusaciones publicadas son muy graves hedabideetan adierazi den bezala

eskatzeko tal como ha quedado reflejado en los medios es necesaria y así lo manifesté

estos posibles casos de cartas bomba enviadas desde las estructuras del estado

garbia eta sendoa da ez ezazu inongo zalantzarik izan es imprescindible investigar este tipo de casos para fortalecer la democracia tantas décadas después la verdad oficial y la verdad real tienen muy poco que ver en casos como entre otros este el asesinato de mikel zabalza

para aldana perdón para legitimar más la democracia

sigue siendo necesario a pesar de los muchos años transcurridos desclasificar estos expedientes no está en nuestra mano

la verdad y llegado el caso reconocer como víctimas de terribles e injustas vulneraciones

o josé antonio cardosa el joven cartero como usted decía de renteria

y lo haremos desde el rigor profesional y la independencia

de la comisión de valoración que está haciendo realidad la ley aprobada por este parlamento que reconoce a las conocidas popularmente como víctimas de abusos policiales

tratar de tapar estas graves vulneraciones de derechos humanos

la valentía y la autocrítica son imprescindibles y cuando sea necesario seguiremos haciéndolo desde una proactiva búsqueda de apoyo a familiares de estas víctimas

antes ahora y siempre seguiremos condenando todas las violencias ya en nuestros retratos municipales entre las fichas de rentería el asesinato de josé antonio cardosa morales junto a rasgos de su vida este retrato le califica como muerto por grupos de extrema derecha o incontrolados

que ya en mil novecientos noventa y seis luis roldán acusó al ministerio de interior del envío de cartas bomba

de la angustia de su madre concha morales como usted bien decía señor arzuaga

recogida en estos retratos lamentablemente tan alejada de la verdad oficial utz iezadazu gure jarrera testuinguruan jartzen

y permítame que ponga en contexto nuestra postura el plan udaberri dos mil veinticuatro plan de convivencia derechos humanos y diversidad es nuestra hoja de ruta

un nuevo escenario un nuevo reto la convivencia en la pluralidad y en la diversidad un nuevo reto al que nos enfrentamos partiendo de nuestra realidad hoy

decididamente asignaturas todavía pendientes y en curso entre ellas especialmente

institucional social y moral de las víctimas de todas las víctimas tanto de las provocadas por el terrorismo de eta como de las víctimas de otras vulneraciones

y el plan del gobierno vasco asegura también que vulnerar derechos y libertades y utilizar el recurso de la violencia con fines políticos debiera concluir con una autocrítica política y democrática porque fue injusto radicalmente injusto y en relación a las víctimas a las víctimas de toda vulneración de derechos

su mirada ha de ser nuestra mirada la de todas las víctimas las víctimas de eta

del uso durante décadas de la violencia terrorista con fines políticos y también las víctimas de otras organizaciones terroristas de extrema derecha como el gal el batallón vasco español

de la violencia por parte de las personas vinculadas a los aparatos del estado todas son víctimas sin equiparaciones sin compensaciones sin exclusiones todas las víctimas sin distinción merecen verdad memoria reconocimiento reparación y justicia

textualmente el estado de derecho está legitimado para hacer frente a los delitos de terrorismo

eso sí de la preservación y garantía de los derechos humanos fundamentales y de los derechos y libertades básicas

y usted sabe que la actuación de este gobierno en materia de reparación de las víctimas de vulneración de derechos humanos lleva muchos años desarrollándose ejemplos de esta línea de trabajo son los cuadernos de memoria y reparación sobre atentados no resueltos desde el punto de vista ni judicial ni policial

de víctimas de otras vulneraciones de derechos humanos el gobierno vasco y la práctica totalidad de los grupos de esta cámara

antonio asunción encajarían en esta ley aprobada por el parlamento vasco y todo esto en coherencia a las líneas de actuación de nuestro departamento que les trasladé

las personas son las bases de nuestras políticas todas las personas todas las víctimas y en este caso son una prioridad todas las víctimas

desde la firme convicción de que no hemos cerrado ni cerramos ni cerraremos los ojos a ninguna vulneración de derechos también en este caso consideramos necesaria la aplicación de los principios de justicia reconocimiento memoria y verdad también en este caso es necesario hacer esfuerzos para acercarnos a la dimensión

porque a partir de la verdad y justicia podremos afianzar mejor la democracia ante hechos que colisionan los pilares de la democracia es necesario investigar

podremos construir una sociedad coherente con los valores y los principios que requiere una sociedad justa y democrática porque necesitamos una memoria plural

para construir un futuro en común una memoria que sirva para no caer en el futuro en los mismos errores del pasado una memoria útil para las futuras generaciones porque a partir de la verdad podremos avanzar en una convivencia constructiva y positiva

justizia eta aitorpena beti la posición de este gobierno es pues clara verdad justicia y reconocimiento

verdad justicia y reconocimiento principios aplicados a todas las vulneraciones de derechos

usted tilda de gravísimas informaciones estas que surgieron la semana pasada

usted se expresó en un acto concretamente en madrid donde fue a explicar el plan del cual ya hablaremos porque va a hacer una comparecencia al respecto y usted se mostró molesta incómoda por las preguntas de un periodista concretamente y hasta que no han sido los periodistas o hasta que no he sido yo mismo el que ha traído este tema la institución ha permanecido en silencio señora artolazabal

comparando con la insistencia en la cual ustedes han realizado interpelaciones como ya nos tienen acostumbrados un día sí y otro también

diciendo a otros cómo tienen que sentir cómo tienen que pensar y cómo se tienen que expresar y yo creo que

y por eso ha contrastado tanto precisamente con el silencio de estos días

que yo creo que se mantiene zuk egiten duzulako interpelazio

sobre el ministro corcuera en una entrevista en el país decía es un hombre transparente un hombre de fiar

ni el hacia mí ni yo hacia él nos ocultamos ninguna carta sabía algo el señor atutxa se lo ha preguntado cuando sucedieron los hechos el psoe estaba ya en el gobierno de lakua

lehendakari con el señor ramón jáuregui como vicelehendakari y ustedes participaban en el pacto de ajuria enea para la normalización y pacificación de euskadi junto con ellos mientras hablaban de normalización y pacificación en euskadi se estaban cometiendo estos hechos

y yo creo que se debería de sentir usted vinculada siquiera indirectamente y que yo creo también que debería hacer una lectura crítica porque creo que se apela mucho al espíritu crítico y por el contrario de lo que hay mucho es espíritu

usted saltó como un resorte ante un acto contra la cadena perpetua que

hace poco tiempo diciendo que era una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y un agravio y revictimización de las víctimas y yo le pregunto si

a favor de las víctimas del estado con los hechos de enaltecimiento que hemos podido ver recientemente

usted me hace un discurso dice que todas las víctimas son iguales

distintas y que hay víctimas que están siendo tratadas de primera categoría

fuera se están dejando al rincón se están dejando en la cuneta y usted me habla en un discurso de que hay que investigar

desclasificar y yo le pregunto más allá del discurso qué está usted dispuesta a hacer cómo va a poner en marcha estas medidas de investigación si va a recurrir a comisiones parlamentarias

cómo va a desclasificar cómo va a poner en marcha iniciativas concretas si se van a evitar nuevos homenajes como los que se practican el doce de octubre qué es

le he recordado cuál era la posición de este gobierno yo no me sentí incómoda para nada ante las preguntas que me realizó un periodista cuando estaba en madrid

interpelando directamente en el ámbito de la memoria de la convivencia

creo sinceramente que decirme a mí que tengo espíritu cínico

del todo inapropiado

cuando sabe usted que yo he defendido a todas las víctimas por igual siempre lo he hecho cosa que ustedes igual

solicitando información y posicionamiento y qué es lo que va a hacer el pnv recordando lo que ha hecho el pnv lo que va a hacer el gobierno

sí que me gustaría que también hiciera esas preguntas

y que me parece que en esa relación estrecha que mantienen estaría bien que también les exigieran porque usted mismo lo ha dicho no en la mesa del congreso

el levantamiento o que se puedan investigar estas situaciones por tanto cada uno tendrá que también ver cuál es

coherente cosa que igual otros no la tienen de la que derivan principios de acción política el primero el de la aplicación de la ley

el reconocimiento legal institucional y social y moral de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos

determinación para impulsar y apoyar decididamente los trabajos de la comisión de valoración cuyos primeros resultados ya los hicimos públicos

a esas personas que habían sido y habían sufrido esa violencia por motivación política es un reto y una conquista y además creo que es un éxito que lo hagamos en términos de verdad justicia y reconocimiento y creo que es por el camino en el que tenemos que seguir trabajando

y este parlamento también quiere en segundo lugar le decía que hablaba de verdad de justicia y de reconocimiento

exigencia de verdad justicia y reconocimiento para todas las vulneraciones de derechos para las de eta y para las víctimas del terrorismo de extrema derecha y claro que sí para las de las vulneraciones de derechos derivados del abuso de poder o de la utilización ilegítima de la violencia por parte de personas vinculadas a los aparatos del estado que es lo que siempre hemos defendido este gobierno siempre ha defendido y los gobiernos anteriores también y creo

me molesta y esa exigencia comienza por exigir que se haga justicia porque estamos en un estado de derecho justicia que en su caso y repito que en su caso debiera llevar a la asunción de responsabilidades de políticas

y a la necesaria sincera y también autocrítica por esa vulneración de derechos humanos

ha sido es y será un objetivo político y ya llevamos y algunos especialmente desde hace mucho tiempo planteando esa reivindicación en términos de exigencia bienvenidas por tanto las voces que se unen a la misma y no es ni debiera ser bandera de nadie

justicia y reconocimiento la futura ley de memoria histórica y democrática contempla ya modificaciones en relación con esta materia que a día de hoy como decía usted se rige por la legislación franquista congreso y senado tienen

ojalá en ese camino en el camino de la denuncia de todas las vulneraciones en el camino de la exigencia de la verdad de la justicia y en el

y reconozcamos todas las vulneraciones de derechos y nos encontremos todos eskerrik asko artolazabal andrea

consejeros señorías desde hace décadas es ingente la cantidad de dinero público gastado en promoción del uso del euskera millones de euros que han hecho posible que un número importante de personas viva gracias a las políticas de discriminación positiva de la lengua vasca política lingüística que está muy lejos de alcanzar los objetivos para los que fue diseñada y aprobada

nuestras dudas de que sean medios de comunicación como deia o como gara

es más en los medios de comunicación que publican en castellano jamás las noticias más destacadas se publican en euskera prácticamente nunca lo que no deja de ser una prueba más de cuál es la realidad en los hogares vascos en los que mayoritariamente se habla español

de engordar estómagos primero agradecidos y después afines y de manejar a la opinión pública haciéndolo antes con los intermediarios en resumen estoy convencida de que la línea de subvenciones a medios de comunicación en castellano para la publicación de noticias en euskera

la posibilidad de demostrarnos que estoy equivocada que financiar medios de comunicación es una magnífica forma de hacer de la lengua vasca

pero temo que los resultados sean los mismos que los de su política lingüística francamente malos si tenemos en cuenta la ingente cantidad de dinero malgastado en ella

años su departamento ha destinado tres millónes de euros a subvencionar el uso del euskera en medios de comunicación que publican fundamentalmente en euskera es decir financiación pública encubierta de periodismo afín a su ideología

ayudas que se reparten en momentos de penuria que también lo son para el periodismo evidentemente y cada vez más dependiente e ideologizado y cada vez más

aún recuerdo el nerviosismo en las filas del pnv cuando en el año dos mil nueve su actual socio de gobierno osó usurpar el poder que ustedes ostentaban desde los tiempos de la transición

en el que debía de ser de todos pero que hasta la fecha parecía propiedad de su partido

después todo quedó en un susto en prácticamente nada pero en su partido saltaron algunas alarmas y decidieron reforzar sus propios medios los que siempre han sido suyos

se convirtieron en martillo de infieles en punta de lanza de su batalla contra el gobernante ilegítimo

que hoy están en la televisión pública es un somero repaso histórico del que además usted sabe mucho porque como buen filósofo ha sido

y director de e i te be hasta que llegó aquel psoe traidor momento en el que dio el salto a la dirección de deia que es el buque insignia del grupo noticias

más o menos afines que para el uso del euskera de hecho es muy curioso que sean precisamente los medios del grupo noticias aquellos que engorden sus arcas con un tercio de las subvenciones que destinan ustedes a la promoción del uso del euskera en diarios radios y medios digitales

es curioso y hasta sospechoso y me baso además en datos del pasado ejercicio en el país vasco subvencionar el uso del euskera es la gran medida destinar dinero público

pero también supone financiar a otros más cercanos a su principal rival en las urnas como es el caso de gara

es común el desprestigio de todo lo español la difusión de la ensoñación independentista

usted mejor que nadie sabe de la importancia del control de la información del control de los medios de comunicación y esas subvenciones para el uso del euskera parecen más una inversión para reforzar a medios afines

y que padecen los rigores de la crisis generalizada del periodismo tradicional porque lo que parece evidente es que el impacto de estas ayudas en el uso del euskera

son muchos los millónes de euros que se están invirtiendo en la promoción de la lengua vasca muchos millónes cada año y con resultados francamente mejorables quizá porque su apuesta es la imposición y no la pedagogía

recién instaurada la democracia el euskera comenzó a ser utilizado como señal de identidad del vasco frente al español

y aún hoy son miles los padres y madres que animan a sus hijos a estudiar euskera porque por mucho español que sepas las facilidades de acceso a un empleo público y a muchos privados

destinar un millón de euros cada año al uso del euskera en medios de comunicación que publican en castellano es pagar favores y alimentar estómagos afines no es invertir en información imparcial ni en promoción de una de las lenguas oficiales del país vasco es detraer

reales de la población más aún en tiempos como los que vivimos en los que deberían enfocar sus esfuerzos en evaluar la política lingüística desarrollada durante años

son tiempos malos para el periodismo peores aún para medios imparciales sin filiación política definida los medios de comunicación todos están viviendo desde hace unos años un difícil proceso de actualización

en otras más acordes con el momento de las redes sociales de la nube de la noticia global pero muchos de esos medios subvencionados como las que destinan cada año para publicar en euskera son garantía de supervivencia y aquí como en cualquier otro sitio no se muerde la mano que te da de comer

esta vía de ayudas dirigidas y teledirigidas y hay muchas necesidades además que atender con fondos que hoy se destinan a la promoción ideológica y de marca

egun on guztioi la línea de subvenciones objeto de esta interpelación

en los medios de comunicación que utilizan principalmente el castellano bien sea prensa diaria o radios de onda y en las agencias de noticias que también difunden noticias en euskera a través de internet

el asunto por el que usted me ha interpelado el pasado ocho de junio el consejo de gobierno aprobó la orden que regula y convoca la concesión de las

posteriormente el día veintidós de junio se publicó en el boletín oficial del país vasco las subvenciones del ejercicio presente dos mil veintiuno no han sido aún resueltas ni concedidas le voy a detallar a continuación el desarrollo que el procedimiento ha tenido hasta ahora

mencionadas de la orden que las regula y convoca así como las fases en las que nos encontramos en este momento el procedimiento

las entidades interesadas disponen de un plazo de un mes para presentar las solicitudes

el veintidós de julio finalizó el plazo de presentación se han recibido trece solicitudes en el mes de septiembre se ha llevado a cabo la comprobación de los requisitos solicitados en la orden tales como nacionalidad o domicilio social

constitución conforme a la legislación vigente actividades que se desarrollan porcentaje de capital público y patrimonio fundacional participación mayoritaria pública en órganos de gobierno y dirección

de las obligaciones tributarias o con la seguridad social

alta en el registro de terceros del departamento de economía y hacienda

no haber sido beneficiario de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística en el marco del convenio suscrito

una vez revisada esta parte se ha dado paso al estudio técnico de las solicitudes

por parte del personal técnico de la dirección de promoción del euskera en esta fase se comprueba el cumplimiento de las condiciones para participar

para realizar el estudio técnico se analizan los formularios presentados descripción técnica del proyecto y presupuesto y relación en papel y soporte digital de las noticias

uno de enero hasta la fecha de publicación de la orden en el caso de prensa y agencias de noticias y la parrilla de programación semanal de las radios cuando se finalice la valoración de las solicitudes se procederá a cuantificar las ayudas por la comisión de valoración y se elevará la propuesta la viceconsejera de política lingüística se prevé que dicha comisión se reúna este mismo mes de octubre

en todo caso las siguientes obligaciones además de las establecidas en el texto refundido de la ley de principios ordenadores de la hacienda general del país vasco en primer lugar utilizar la subvención para el concreto destino por el que ha sido concedida

la presencia del euskera en sus publicaciones y programaciones en segundo lugar ejecutar íntegramente el proyecto previsto en la solicitud

facilitar cuanta información sea requerida por la oficina de control económico y por el tribunal vasco de cuentas públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización

de su uso cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de propiedad intelectual derechos de autor depósito legal distribución etcétera respetar los derechos humanos y los valores de convivencia entre las personas respetar la libertad de expresión e información no hacer

del lenguaje y de los roles de hombres y mujeres de acuerdo a la ley de igualdad entre

y acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las personas adjudicatarias así como de las obligaciones frente a la seguridad social como todas las convocatorias

concedida cuando llega el momento de justificar la subvención recibida en este caso treinta y uno de marzo de dos mil veintidós si se apreciara

podrá dar lugar a la modificación de la resolución si se diera el caso de que no se ejecute el proyecto en su totalidad se procederá a su reintegro

independientemente del importe de la subvención concedida toda entidad queda

ante la dirección de promoción del euskera la ejecución del proyecto subvencionado el plazo para ello es el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós

y se examinará la siguiente documentación en ese momento memoria del proyecto

declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención

relación clasificada de los ingresos correspondientes copia de las facturas o documentos que acrediten

antes relacionados con los asuntos antes mencionados una relación de las noticias y reportajes publicados en euskera a lo largo del año

subvención la dirección de promoción del euskera podrá solicitar cualquier otra información complementaria que considere oportuna este es el modo de proceder en la concesión y seguimiento de las citadas subvenciones así se ha actuado en las convocatorias anteriores y así se procederá también en esta

gracias señora presidenta voy a ser muy breve en este turno de réplica porque además ya es tarde estamos todos cansados y creo que su desinterés señor zupiria es más que evidente pero le voy a decir una cosa un millón de euros al año

los datos que le he dado además son del año dos mil veinte no del año en curso y además son datos que ya están reseñados mi pregunta es qué medios de comunicación han sido los que más han recibido si yo no me equivoco el grupo noticias verdad curioso subvencionar el uso del euskera en medios de comunicación que publican en castellano a juicio de vox es tirar el dinero y digo a juicio de vox porque para ustedes es otra cosa evidentemente es control de la información que ofrecen medios dependientes también es financiación de medios afines a la ideología nacionalista

es gasto superfluo desde luego evitable y por supuesto absolutamente innecesario

los que concentrarían la mayor parte de estas subvenciones sin olvidar también a los otros medios algo escorados hacia la izquierda

y sabe cómo está el panorama ahora lo sabe cómo de dependientes pueden ser los medios en tiempos de profundas crisis como los que sufre el periodismo desde hace ya unos cuantos años

además por supuesto de la experiencia le anuncio que usted ya sabe lo que vamos a hacer invitar a este parlamento a que eleve al gobierno vasco la exigencia de acabar con estas subvenciones que muy lejos están de lograr el fin para el que dicen estar diseñadas una nueva oportunidad para que hagan gala de su nulo talante democrático

y que nadie se escude en lo que desafortunadamente alguien denominó en esta cámara

porque ni yo ni vox tenemos nada en contra de cualquier lengua en uso menos aún en contra de una que la propia constitución reconoce como cooficial en el país vasco lo que sí tenemos auténtica fobia es a la imposición a su insistencia

transformando lo que debería de ser un mérito el conocimiento de una lengua en una forma de discriminación de aquellas personas que no pueden acreditar determinados

de quienes han defendido con todos los medios a su alcance acabar con el español con todo símbolo de nuestra nación el euskera ha sido seña identitaria

la supervivencia de medios de comunicación independientes e imparciales

así desde luego nada que ver con lo que ustedes pretenden consolidar un panorama mediático dependiente ideológica y económicamente de su gobierno ciertamente les va muy bien mucho han aprendido desde aquella dura legislatura en la que estuvieron alejados del poder

con su buque insignia e i te be y sus fieles aliados

a ustedes les va bien a la promoción del uso del euskera creo que no tanto a la ciudadanía aún menos este millón de euros que gastan en control mediático repito en control mediático debería tener otro destino que son muchas las necesidades que ahora mismo hay que atender

ayuda a llegar a fin de mes que eso es lo que necesitamos todos los ciudadanos muchas gracias eskerrik asko martínez andrea zupiria jauna

presidente andrea martínez andrea es función y obligación del departamento de cultura y política lingüística

impulsar y desarrollar programas para el fomento del euskera en la sociedad y la línea de subvenciones por las que usted me ha interpelado se enmarca plenamente

al menos al año dos mil siete en dos mil diecinueve le dimos un nuevo impulso tanto en importe como en criterios porque creemos que los medios de comunicación juegan un papel clave en la normalización del euskera

interesados en esta subvención están haciendo un esfuerzo importante

y equipos de trabajo por el interés que tienen en ofrecer a sus públicos y audiencias un producto más completo y diverso con un valor añadido

pero no solo estamos cumpliendo el objetivo de ofrecer a la sociedad contenidos y espacios informativos en euskera también contribuimos

de trabajo en nuestra opinión con la incorporación y presencia del euskera en los medios de comunicación que utilizan principalmente el castellano ganan

y ganan también los propios medios y en la base de todo ello está el derecho a recibir la ciudadanía también en euskera así lo fijó la ley del euskera de mil novecientos ochenta y dos que dedica varios artículos a esta cuestión

en su artículo veintidós se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a ser informados por los medios de comunicación social

y a tal efecto dispone que el gobierno adoptará las medidas conducentes a aumentar la presencia del euskera en los medios de comunicación social tendiendo a la equiparación

oficiales en su artículo veintitrés determina que el gobierno promoverá el empleo preferente del euskera en los medios de comunicación de la comunidad autónoma a fin de garantizar la equiparación de ambas lenguas en el artículo veinticinco

de forma progresiva el derecho reconocido en el artículo antes citado adoptará las medidas encaminadas a la promoción y protección del uso del euskera potenciando en todo caso su difusión y posibilidades de utilización efectivas

la prensa y publicaciones cinematografía teatro y espectáculos

un acuerdo internacional ratificado en estrasburgo en el año mil novecientos noventa y dos

incluido el estado español incorpora este objetivo de la defensa y promoción de las lenguas de todas

en su artículo once dedicado a los medios de comunicación dice textualmente que se deberá fomentar y o facilitar la publicación de artículos de prensa

regionales o minoritarias de manera regular y que se deberán cubrir los gastos adicionales de los medios de comunicación que utilicen lenguas regionales o minoritarias cuando la ley prevea una asistencia financiera en general

estas subvenciones señora martínez van en la línea de fomento del uso y conocimiento del euskera

de su uso también en los medios de comunicación los medios de comunicación en todos los niveles en todos los países y en todos los idiomas atraviesan

como en los hábitos de consumo se enfrentan a un escenario futuro

y a la vez a las democracias europeas se les antoja más necesario que nunca contar con medios de comunicación fuertes sólidos e independientes que sean capaces de adaptarse a esas transformaciones y también a la garantía del sistema democrático frente a los discursos populistas la mayor

en ese sentido en su compromiso de ofrecer una información profesional y de calidad

garantizar la presencia del euskera en esa realidad eskerrik asko

buenos días señora presidenta buenos días señor consejero el pasado seis de octubre el mundo del cine se quedó de piedra al ver las medidas que el gobierno había adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria

en esta nueva normalidad les impedía realizar su actividad de forma normal desde esa fecha los cines de euskadi que no los del resto del estado tienen prohibido consumir bebidas y comida exceptuando agua qué razón ha llevado a tomar tal decisión

por qué en los meses anteriores sí se podía comer y viven en los cines y a partir del seis no se puede

de pandemia han sido muchas las medidas que las instituciones vascas

preservar la salud y gracias al equilibrio entre las medidas sanitarias y aquellas que han condicionado nuestra normalidad ha sido posible

ahora gracias a la vacunación y a la eficacia de las medidas adoptadas

recuperando casi totalmente la normalidad en nuestras vidas

el mundo siga todavía en estado de pandemia el pasado siete de octubre el lehendakari decretó el fin de la situación de emergencia sanitaria y el departamento de salud fijó una serie de normas que se mantendrán en vigor mientras los criterios de salud pública así lo dispongan

aforos al cien por ciento en todos los espacios sean abiertos o cerrados

largamente demandada por el sector en atención a las dificultades que las salas de cine han atravesado la dirección de salud pública del gobierno vasco ha optado por eliminar la exigencia de mantener una distancia de metro y medio entre las personas que acuden

de otra manera si no es posible mantener la distancia interpersonal señor angulo deberemos ser especialmente exigentes con el uso de la mascarilla e insistir en que se debe usar de forma continua y permanente en el interior de las salas la ingesta de alimentos o comida

de la mascarilla y según el criterio de la dirección de salud pública

especialmente en una sala con el aforo completo como no ha sido posible hasta ahora yo durante este año y medio no he discutido una sola de las propuestas que los responsables de nuestra salud han realizado y no lo voy a hacer ahora he trabajado y he tratado de entender
y recomendar su cumplimiento y eso es lo que pienso seguir haciendo ahora también eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna angulo jauna zurea da hitza

responsabilidad a la hora de tomar las medidas necesarias que ha implantado el gobierno vasco con objeto de

fiel reflejo de ello es el dato incontestable de que en dichas aulas

y esto ha sido posible gracias a la enorme diligencia con la que han desempeñado su trabajo a pesar de ello los exhibidores uno de los sectores que más han sido afectados sus pérdidas alcanzan los quince millónes de euros

que parecían mejorar las expectativas la prohibición de comer y beber en las salas de cine es un fuerte mazazo que les

en el mejor de los casos y es que el consumo de palomitas caramelos o refrescos supone como un veinticinco por ciento de la recaudación del cine y por tanto es un elemento fundamental para su viabilidad económica esta nueva restricción

es ilógica y contraria a criterios epidemiológicos va a provocar que la recuperación

que estaba empezando a vislumbrar el sector sea

creo que no es el momento de poner piedras en el camino de la recuperación cultural sino todo lo contrario

la reactivación del sector y que los espectadores vuelvan a las salas

si realmente cree que es necesario restringir el consumo de

los meses de julio y agosto cuando la incidencia era superior a ochocientos casos

estaba permitido y ahora que la incidencia es de cincuenta no está permitido qué recursos tiene pensado arbitrar o poner en marcha el departamento o va a dejar que sean las propias salas y los

los que vayan siendo los vigilantes de que se cumpla la normativa ustedes saben que nosotros nuestro grupo también ha venido apoyando todas las medidas de prevención sanitaria que el gobierno ha ido tomando a lo largo de toda esta pandemia

de todos los grupos políticos y entendíamos también que la situación era especialmente dramática necesitaba cohesión política y determinación ahora bien

mínimo de coherencia y esta a nuestro entender no la tiene y ustedes lo saben perfectamente qué sentido tiene que en un bar la gente esté comiendo y viviendo codo con codo y hablando sin mascarillas

aire acondicionado y todos mirando en la misma dirección

filmena se trata de una nueva convocatoria de ayudas que lanzaremos este mismo mes con una dotación de doscientos mil euros dirigido a las empresas exhibidoras podrán recibir hasta quince mil euros los cines de tres o menos salas

esta convocatoria se suma a otras ayudas que hemos destinado a este sector durante este mismo año como el programa

de las subvenciones que zineuskadi destina a las salas de cine

somos conscientes de las circunstancias que el sector de las salas de cine ha vivido este año y medio de pandemia y por eso no haremos siendo sensibles
y trabajando con ellas eskerrik asko eskerrik asko